comenzar diciéndole que por el respeto que nos merece esta cámara y los debates que aquí se sustancian vamos a abordar voy a abordar este debate con ese rigor y con ese respeto

de la responsabilidad institucional pero créame que me resulta complicado

de esta manera no porque usted no me inspire ese respeto que usted sabe que no es así

sino porque este debate es un debate que ya lo hemos traído a esta cámara hasta la extenuación y yo puedo entender

es hasta legítimo pero eso no obliga

política y que quiere trasladar además de la manera fidedigna posible con todo lo que eso supone la realidad de lo que está sucediendo en la política catalana a la realidad de la política vasca porque claro el señor urizar

a lo que está sucediendo en cataluña ojalá pudiéramos estamos bombardeados permanentemente por este debate estamos bombardeados desde

nadie le da la espalda lo que sucede es que estamos en un proceso de agotamiento ya que no solo se produce en el resto de españa

social y político experimentado de manera creciente semana a semana en la propia cataluña y experimentado en la piel de los propios catalanes

es nada más y nada menos que la creación de una comisión especial para el estudio de los efectos del proceso soberanista en la comunidad autónoma del país vasco es decir

creemos en este parlamento una comisión para que los parlamentarios nos sentemos a ver qué pasa en cataluña claro esto suena bastante surrealista desde nuestro punto de vista porque además es verdad que usted está amparado por el reglamento se

estas comisiones especiales se podrán constituir en el parlamento para aquellos aspectos que afecten directamente a la sociedad vasca usted se ha esforzado aquí para argumentar y para explicar cómo afecta directamente a la sociedad vasca peros son argumentos que en cualquier caso están traídos por los pelos y estoy hablando de una cuestión estrictamente formal si me lo permite

de esta intervención porque entonces caben dos preguntas la primera es existe un proceso soberanista en cataluña y segundo esto afecta a la sociedad vasca

de tal manera que justificara la creación en este parlamento de una comisión especial para que nos dediquemos a estudiar los efectos

es verdad que según los independentistas existe un proceso soberanista no hay más que oír a los independentistas en cataluña

no a cataluña a los independentistas en cataluña

tengo que decirle que según el estado de derecho no existe existe

lo que estamos teniendo oportunidad de ver a veces con sorpresa otras con cierta hilaridad

en cataluña es una cosa completamente diferente a un proceso ordenado a un proceso fruto del entendimiento del acuerdo de la búsqueda de consensos

estamos viendo un despropósito jurídico y esto lo avalan

pero a día de hoy es el árbitro en nuestro país

lo que está sucediendo es un proceso profundamente antidemocrático

de las leyes de las que nos hemos dotado para convivir no hay posibilidad de entendimiento

algo un procedimiento en este caso lo que ustedes llaman proceso como democrático

de guerra como manifestaba y reconocía y expresaba con mucho regocijo

pero en guerra una terminología que en democracia y en sociedades avanzadas

el grado ya de esquizofrenia política el que se ha llegado en cataluña

estamos ante un atropello democrático legal

un atropello a la democracia un atropello al entendimiento y ustedes pretenden que aquí nos constituyamos en comisión especial para hablar sobre esto afecta a la sociedad vasca los vascos afortunadamente somos sensibles a lo que nos suceda

somos una sociedad muy politizada también en el aspecto positivo y también en el negativo afecta probablemente al conjunto de españa y una reflexión un debate

pero de lo que tenemos que conseguir aquí a nuestro juicio es no solo que no nos afecte sino que no nos infecte

que no nos infecte la actitud de los políticos y responsables nacionalistas catalanes

sea algo muy diferente de lo que fue hace pocos años

cataluña que era ejemplo de entendimiento de progreso de acuerdo que era incluso

que era capaz de que convivieran en su seno las identidades

que era capaz de que conviviera con naturalidad y normalidad diversas formas de entender y de sentirse catalán hoy desgraciadamente las tornas se han invertido y hoy cataluña vive

un clima de cierta crispación social evidente crispación política

pero no hacia los del resto de españa sino a los propios políticos en cataluña yo creo que los vascos tenemos que aprender y tomar buena nota y para eso no necesitamos una comisión especial necesitamos aprender y tomar buena nota de cómo no hacer las cosas

no es que no se lo piense dos veces sino que huya de cómo no hacer para que otras comunidades autónomas

no solo de personas sino también de capitales de cómo hacer para que la política sea edificante y no se convierta

sin solución de continuidad porque se han embarcado en un recorrido y por un camino que solo lleva al enfrentamiento y que solo puede llevar a través de callejones sin salida

a malas consecuencias lo que sucede lo que está sucediendo en cataluña y termino ya

desde el resto de españa como decía antes con interés con preocupación a veces con hilaridad

objetiva es que lo que está sucediendo en cataluña por responsabilidad fundamentalmente por responsabilidad de los políticos independentistas es que cataluña está peor de lo que estaba hace veinte años mire yo lo he dicho en alguna ocasión y se lo voy a repetir

yo creo que algo sucede mal cuando la cataluña del noventa y dos por ejemplo

podemos acogernos con cierta facilidad una cataluña de convivencia de progreso y de ejemplo

la política ha deteriorado cataluña la política en cataluña hecha por los políticos catalanes ha deteriorado no solo la política en cataluña sino la convivencia y el clima social en cataluña yo estuve este fin de semana pasado en cataluña y le puedo asegurar

no ya la independencia sino sí que se pudiera votar hoy está harta harta de la independencia

la educación la protección social la sanidad

con los independentistas catalanes por eso nuestro voto entre otras cosas va a ser negativo gracias eskerrik asko

gracias presidenta bueno hoy es en pleno

la anterior fue una foto no sé cuál es ahora la fórmula que bildu usará para traer la próxima semana la estelada a este parlamento pero seguro que algo encontrará pero como no escuchamos tampoco nada nuevo en este sentido

nada que no vengamos repitiendo hasta la saciedad y que creo que es lo que una mayoría de vascos y vascas validó hace muy poquito tiempo seis meses en este país

ni rupturas va a ser acuerdo pacto y legalidad

nos parece que está de más un foro para hablar de las consecuencias de la discusión abierta en cataluña

pero nos parece que se hace más como excusa que como convicción porque dudamos mucho

que pueda tener para nosotros lo que discuten allí dudo mucho que quieran analizarlo

antes de hacer ningún análisis y la conclusión de ustedes es que los vascos debemos de seguir sí o sí esa misma vía se lleve lo que se lleve por delante por de pronto

servicios públicos derechos sociales una decisión regeneradora de sus instituciones después de que los jueves hayan considerado que los rectores catalanes se han guiado por intereses que tenían muy poco que ver

y tampoco creemos que la intención de bildu sea la que dicen tener con esta comisión sino reiterar su discurso intentar poner en algún aprieto que otro al partido nacionalista vasco y los socialistas vascos vamos a reiterar nuestra posición nuestra apelación permanece al diálogo entre gobiernos

para encauzar por las vías legales las diferencias que existen porque las diferencias políticas que existen es cierto son la razón de ser de la democracia que es como

no ante tribunales nosotros compartimos sin matices la posición que mantienen allí nuestros compañeros catalanes del psc y su permanente apelación al diálogo

que es la que nosotros hemos querido aplicar aquí en euskadi y eso es lo que nos está permitiendo en euskadi que dediquemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en ofrecer soluciones a los ciudadanos y no en crearles nuevos problemas y a que todos los acuerdos respondan a criterios de seguridad jurídica y por lo tanto de legalidad porque la ley no es una imposición

sean de españa de euskadi o de cataluña y supone mayorías

y respeto a las reglas de juego las dos cosas no vale lo uno

y eso aquí lo tenemos por desgracia bien aprendido y bien escarmentado cuando se pasó la fiebre empezamos a reconocernos otra vez como lo que somos como una sociedad plural con diferentes sentimientos e identidades y una vez que reconocimos eso y nos quitamos el lastre de quienes mataban a quienes expresaban públicamente esas diferencias pudimos transitar de nuevo por un espacio de entendimiento entre diferentes que es lo que siempre ha dado en este país los mejores frutos para los ciudadanos vascos como allí debía hacerse para los ciudadanos catalanes no para las ensoñaciones de algunos

y creemos sinceramente que nos va mejor mucho mejor que en cataluña a qué viene rectificar y volvernos a reflejar en espejos rotos como el de cataluña por qué una comisión para cataluña y no otra para kosovo o para escocia o para quebec o para el brexit

porque puestos a evaluar efectos podemos transformar este parlamento en vez de en una cámara legislativa y de impulso contra el gobierno

y nosotros no aspiramos a ser ejemplo para nadie no hacemos las cosas para que se nos admire en el mundo pero cuando las instituciones europeas no tienen ningún interés ninguno en lo que les puedan contar las autoridades catalanas y sin embargo sí quieren conocer

o nuestro modelo social quienes tienen que pensar en los efectos de sus decisiones son otros

queremos adaptar para el futuro este esquema que ha funcionado gracias a nuestro auto gobierno a nuestra capacidad de pactar

y en esas estamos bildu nos propone una comisión para mirarnos en ese espejo roto catalán y cataluña si el sentido común y el diálogo no lo remedian lo vemos ya en el espejo retrovisor en lo que queda atrás en ese modelo que pretende sobreponer la patria a los ciudadanos

ese modelo de órdago que desde luego no sirve para atender a la gente en el ambulatorio

ni protege mejor al que lo necesita pues no de ahí no tenemos nada que imitar no tenemos conclusiones que sacar de los desafíos de saltarse las reglas que uno mismo ha pactado de la falta de determinación para depurar las cañerías internas de un sistema contaminado del que hacen

que solo pretendían montar un pollo nada que aprender de quien apela a la urna de forma recurrente

nada de quienes simplifican sus posiciones para confundir a los ciudadanos para ponerles ante un sí o un no en cuestiones que sus representantes son incapaces de resolver

de lo que hay que hacer eso es la antipolítica eso es lo que hace trump en estados unidos y lo que hace le pen en francia antipolítica

y los socialistas hemos decidido hacer política política pura

y hacerlo junto a otros que piensan distinto de nosotros

se pacta con quien piensa diferente ese es el valor de la política y el valor de los acuerdos

y hacerlo de común acuerdo y claro que hay problemas que hay carencias en nuestro autogobierno que podemos mejorar y que estamos dispuestos a hacerlo respetando el ordenamiento jurídico vigente esa ha sido la apuesta de los socialistas vascos hemos encontrado una vía vasca una vía propia ha costado pero vamos a seguir apostando decididamente por ella y deseamos que los catalanes

desde sus particularidades en la que el diálogo y el acuerdo sustituyan a los monólogos permanentes y a las rupturas aquí hemos sido capaces esperemos que allí también no creemos que les ayude este altavoz continuo

porque cada vez que lo hace lo que consigue es lo contrario reforzar la idea

mucho más práctica y más eficaz en una comunidad de fuertes sentimientos identitarios como es esta que la pluralidad se puede y se debe administrar desde la legalidad

se sientan partes de una misma comunidad eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

han sido ya unas cuantas veces las que ante la fijación que algunos partidos tiene con determinados temas pues hemos utilizado expresiones populares para describir en este pleno ocurre y hoy tengo un ejemplo una expresión que sería

son unas cuentas veces ya las que en estos pocos meses se ha discutido sobre cataluña que es totalmente legítimo y en el seno de esta cámara no solo eso sino que han sido varias veces y varias las declaraciones conjuntas que hemos firmado algunos de los partidos aquí presentes en relación a las vulneraciones democráticas que se están dando en cataluña que existen

y que le diría también al señor sémper que lo que es profundamente antidemocrático precisamente es la actitud

dando la espalda a cualquier oportunidad de diálogo con cataluña pero hoy de lo que se trata es de traer una iniciativa que yo creo que va dirigida a la parroquia de algunos para aprovechar también a hablar no solo del tema que nos trae que es cómo afecta el procés catalán

cualquier cuestión que tenga que ver con el estado español que repito que es respetable y legítimo pero quizás resulta un tanto repetitivo

más que clara pero entrando al fondo de la cuestión el análisis del proceso soberanista catalán es un análisis que es principalmente político

es objetivo que se está dando un proceso político pero es difícilmente objetivable este proceso político

en nuestro caso además contamos con una organización homóloga presente en cataluña con cuyos criterios nosotros coincidimos

sino por partir a nuestro entender de un buen análisis de aquella realidad y del día a día político que se lleve en cataluña compartimos una solución a la situación que allí se da y como saben todos no es otra que respetar

pactados que requieren de amplias mayorías para llevar a cabo modificaciones del estatus y que unen la cuestión territorial a cuestiones de índole social en definitiva una solución de clara inspiración en otro modelos como pueden ser el canadiense

por su grado de desarrollo humano y por lo asentado de una conciencia ciudadana democrática pero hoy

que es también el debate que se ha intentado traer y siento deciros que algunos habéis caído además en ello o sea se ha caído en debatir otra vez sobre cómo se ve el

sino de si este nos afecta cuánto y cómo y sobre todo de dónde abordar estas cuestiones dentro de la cámara

hay una ponencia de autogobierno que ya existe y que recuerdo que

al derecho a decidir no necesitamos crear un nuevo espacio para abordar estas cuestiones

solicitar que se elaboren informes si fueran de interés de la ponencia

ágil y eficaz si resulta que puede alimentar o ayudar de alguna manera esa comprensión al proceso que aquí se está dando

es sencillamente esta razón por la que votaremos en contra de esta proposición no de ley al igual que hicimos con una enmienda presentada a los presupuestos del gobierno vasco

en el seguimiento del proceso soberanista catalán sinceramente por nuestra parte no hay mucho más que decir no estamos por la labor de volver a repetir debates que ya hemos tenido sobre el procés creo y lo digo

en las últimas semanas desde que ya tuvimos un debate sobre esta cuestión nuestra posición a favor del derecho a decidir es clara

y es clara nuestra predisposición hasta abordar esta cuestión donde procede en la ponencia de autogobierno poco más creo que se puede añadir salvo que lo que se busque sea es tener

para algún grupo a cuenta de un debate ya tratado en los últimos meses no una ni dos ni tres veces eskerrik asko eskerrik asko

diagnostikoa el deseo de cataluña de decidir su futuro político se ha hecho cada vez más evidente ante el mundo hasta el punto de convertirse en una aspiración sostenida que hoy acoge la voluntad de una gran mayoría de su población entre los derechos esenciales

de las sociedades democráticas se reconoce el de decidir su futuro político y es este mismo derecho el que sustenta la petición de una mayoría de ciudadanas y ciudadanos de cataluña que quieren materializarlo mediante un referéndum no está hablando de proyectos concretos está hablando de consultar de referéndum

no ya personas sino entidades privadas jurídicas pasando desde artistas empresarios el

dicen ponemos de manifiesto que la voluntad de expresión de las

y congruente con la determinación cívica pacífica y democrática que han expresado las multitudinarias movilizaciones de la sociedad organizada a favor de su derecho a decidir

izan beharko da por todo

instamos a los gobiernos de cataluña y del estado español a superar las dificultades políticas y los apriorismos y alcanzar finalmente el acuerdo que establezca las condiciones y las garantías justas y necesarias para la celebración de un referéndum reconocido por la comunidad internacional

vinculante y efectivo reconocemos al parlamento de cataluña como la institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país por eso

para la articulación de este referéndum manifestamos la convicción de que el referéndum es un instrumento inclusivo que permitirá

de las diversas posiciones que los ciudadanos y ciudadanas de cataluña han expresado respecto a la relación política de cataluña con el estado español afirmamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos y lo hacemos apelando al mecanismo fundamental

el conocimiento y la validación de la voluntad mayoritaria del pueblo que se expresa con el voto eta azkenik erreferendum honek guztiek

señor martínez yo discrepo de usted en una cosa a ver varias

voy a hacer un esfuerzo por intentar refutarlo esto de que el gobierno del partido popular da la espalda al diálogo es algo que además en buena medida es una tesis que ha defendido el señor egibar no solo ustedes dos sino que es algo compartido claro es que

una cosa es el diálogo y otra cosa es el trágala es decir cuando a uno le dicen oiga mire

del mes tal voy a poner unas urnas voy a saltarme la ley voy a intentar romper el consejo constitucional estatutario

haga usted lo que haga me dé los argumentos que me dé haga usted el pino puente esto va a pasar

porque cuando uno quiere dialogar cuando uno quiere buscar el entendimiento y el acuerdo no plantea trágalas ni además dibuja la estación término a la estación término se llega en función de dos personas o dos instituciones que discuten o debaten

trazan un recorrido para llegar a un final consensuado y acordado y esto no es lo que se está planteando por parte del gobierno de cataluña por parte de los partidos nacionalistas

que antes ha podido haber todo tipo de responsabilidades de análisis de reflexiones que podamos o incluso hasta de seguro pero lo que se planteó hoy día

cuándo surge todo esto señor urizar cómo estamos aquí

también es otro de los mantras el partido popular no salió aznar afortunadamente pero

del parlament de catalunya luego no fue así bueno hay muchos argumentos pero yo creo que hay un

pasar por alto cuando en el mes de junio del año dos mil once en aquel contexto de exaltación social derivado del quince mil también se rodea el parlament de catalunya

en el que hasta entonces la reivindicación de los políticos catalanes independentistas no era esta de la independencia ni el referéndum

hablemos de la financiación autonómica hablemos de posibles hipotéticas reformas del estatuto es decir este era el clima de reivindicación

el president mas y otros consejeros incluso algunos diputados tengan que acceder y salir

cuando resulta que la sacrosanta inviolabilidad de los nacionalistas y de los independentistas salta por los aires porque salta también

y se centra en un debate social económico y de gestión de la crisis económica amén también de la corrupción especialmente de la corrupción también habida en cataluña institucional como estamos teniendo la oportunidad de ver

cambia y fíjense qué hábiles han sido para que en todos estos años ya no haya debate social económico

ya no haya un debate sobre cómo se gestionan los servicios públicos en cataluña

en la sanidad sobre la calidad de la educación sobre la protección social todo eso ya no existe en cataluña el único debate

proceso han sido muy hábiles los dirigentes independentistas han sido muy hábiles en desviar el foco de debate y el foco de atención aunque se haya llevado a algún partido político por delante aunque se haya llevado alguna tradición política también por delante una tradición de entendimiento de consenso

estamos mejor o estamos peor cataluña es un ejemplo más edificante hoy que en el año ya no voy a decir noventa y nueve otra vez por no repetirme que el año dos mil o es un ejemplo

nosotros defendemos que es un ejemplo del que huir y por eso le decía que lo que tenemos que intentar no es que no nos afecte es que no nos infecte políticamente hablando

y esa forma de entender la política y esa forma de entender el ejercicio de una responsabilidad tan alta como es el gobierno muchas gracias eskerrik asko

si me permite desde el escaño porque voy a ser muy breve esto está muy manido y muy sobado y son ustedes muy pesados señor urizar y muy insistentes pero es evidente

caer del burro por lo tanto no hay mucho más que decir pero sí le quería dejar dos notas sobre la situación catalana usted que va mucho a cataluña

y no conoce mucho más de lo que pasa en cataluña y en cataluña hay muchas más realidades que la que usted conoce

pero se han creado dos sociedades que viven en vías paralelas

una que piensa solo en catalán solo en independentismo y solo en el proceso y en nada más y la otra parte por cierto cada vez más grande que se preocupa de los problemas que le preocupan a todo el mundo la salud la educación la calidad de los servicios públicos la vivienda

una encuesta en periódicos catalanes que el sesenta y uno por ciento de los catalanes están en contra de una declaración unilateral de independencia váyanselo pensando

al señor pastor la brevedad porque ha sido el primero esto no le voy a referir a él pero al resto se lo voy a decir que habéis caído en esta cuestión

muy claras ya un recordatorio al señor sémper recordarle algunos diputados salieron en helicóptero pero otros muchos salieron andando por la puerta también o sea que vamos a recordar la realidad

le voy a decir que respecto a los recortes en cataluña algunos vienen de madrid tienen que ver con la financiación autonómica sí pero no nos equivoquemos

y los recortes prevalecen porque en cataluña la izquierda y la derecha han pactado una vez más poniendo lo nacional muy por encima de lo social la izquierda con una derecha tan corrupta como la de madrid y haciendo así que priorizando lo nacional sobre lo social y no entrelazándolo prevalezcan

de derechos y de vulneraciones sobre nuestros servicios públicos que no se están revirtiendo en cataluña

que se reviertan todos los recortes que están sucediendo los servicios públicos en cataluña en educación y en sanidad principalmente egibar jaunari

ze papera qué papelón con la puñalada

planteándoos como la parte buena del nacionalismo la parte sensata y

haciendo ese planteamiento que es haciendo durante hace dos o tres semanas hacer la defensa que se ha hecho hoy
del procés por tu parte tela eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

me has obligado a salir hombre ese sí que es el esquema en el que

maniqueo de vascos buenos catalanes malos en determinada época y al revés katalanak

elkarteak eta ere adibidez kaleratzerik ez plataforma ezberdinak después de muchísimos años de pelea de

de organizaciones de consumidores de plataformas anti desahucios el tribunal supremo en el año dos mil trece sentenció que esas cláusulas eran abusivas

cláusulas abusivas y poco transparentes pero tenían una

la falta de retroactividad esa falta de retroactividad fue solucionada más adelante por el tribunal de justicia de la unión europea hace poquito el veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis que

a miles y miles de personas en el estado y a miles de personas también aquí en euskadi en ese momento es cierto que el gobierno del estado

se cobraron de una forma indebida por parte de las entidades bancarias

que ese gobierno fue rápido en este tema pensamos y por eso no saludamos tampoco ese decreto en su conjunto que ese decreto tiene importantes deficiencias por ejemplo

decir de una forma llana que se pueda cambiar por productos bancarios si

suelo con el único objetivo de ganar más dinero en una época de crisis también

cabe pensar sinceramente que salvo honrosas excepciones muchos de ellos estén pensando en ofrecer productos de dudosa rentabilidad

de ciudadanas también ese real decreto no obliga a los bancos a comunicar directamente a los posibles beneficiarios de esta posibilidad de devolución del dinero

hay varias sentencias que así lo avalan pensamos que desde el gobierno se tiene que ser bastante más exigente con ellos el sistema bancario

de euros la propia asociación española de la banca dice que la devolución de las cláusulas suelo puede suponer

millónes creo que no es tanto para el conjunto del sistema bancario y creo que cada devolución individual a cada familia o a cada persona trabajadora

por las cláusulas suelo puede suponer mucho lo que para unos pocos que son los bancos no es tanto para

mucho otros elementos también que quedan de una forma

dominante es con el cálculo de las cantidades indebidamente pagadas por los ciudadanos y las ciudadanas

de la devolución de las cláusulas suelo se establece que los bancos son los que calculan esa cuantía

se lleva a juicio solo si el banco pierde el cliente no tendrá que pagar las costas estamos entendiendo que si las costas estamos hablando entre dos mil tres mil cuatro mil

asumir un riesgo de perder cierta cantidad de dinero que para los bancos vuelvo a decir no es en absoluto ningún roto en su cuenta de

por tanto por una parte saludamos esa sentencia del tribunal de justicia de la unión europea pero somos críticos con muchos de los contenidos de ese real decreto ley y ahora hablando también de las competencias que tiene el gobierno vasco y del papel del propio gobierno y de este parlamento en esta transacción

como tienen hemos alcanzado entre cuatro grupos parlamentarios es ampliar y mejorar los servicios de kontsumobide el instituto vasco de consumo

es verdad que hay una sección en la página web que las oficinas municipales y las oficinas territoriales tienen esta información pero pensamos que se puede hacer muchísimo más y se puede hacer también mucho mejor y además aprovechar un tema que afecta a tantos ciudadanos a miles y miles de personas en euskadi

es necesario que se despliegue por tanto este organismo este servicio de asesoramiento a través de las propias oficinas municipales como decía a través de las oficinas territoriales pero también pensamos que como para tantas otras cosas se hace también propaganda institucional

deberían de ser también altavoz de los servicios de kontsumobide de los servicios que podemos ofrecer a nuestros ciudadanos y ciudadanas porque necesitamos como decía

también la mediación entre los afectados y las afectadas y las entidades bancarias porque insisto a las entidades bancarias

a los ciudadanos y pensamos que desde las administraciones públicas tenemos que ayudar a estas personas y también como organismo de consumo impulsar medidas de control de los productos que se estén ofreciendo a los clientes en euskadi y también

a la hora de recibir esas denuncias por parte de la ciudadanía y también de canalizar esas denuncias de productos de dudosa

esos ciudadanos que también se impulsen medidas de sanción en el caso que así

acabamos esta transacción con una propuesta que a nosotros evidentemente desde nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos

a la propuesta que traíamos en el día de hoy que es la reforma de la ley hipotecaria evidentemente y aprovecho hoy para decirlo aquí que defendemos que en esa reforma de la ley hipotecaria y del conjunto de las leyes que regulan la vivienda en el estado y también en las diferentes comunidades autónomas

de los desahucios o la amortización de la deuda con la entrega de la vivienda o la prohibición taxativa de los desahucios en primera vivienda claro que sí

en este tema concreto ya vamos a traer más adelante también iniciativas en este sentido hemos conseguido llegar a un acuerdo entre los cuatro grupos parlamentarios

de una manera lo más mayoritaria posible se apruebe en el congreso aumentar los controles y la transparencia sobre los productos hipotecarios nos parece

que la firmamos la llevemos también al congreso de los diputados y allí nuestros grupos también la tramiten y peleen porque se apruebe en los términos más de control más de transparencia para facilitar

del hacer una hipoteca se haga de una forma muchísimo más transparente

los derechos de la ciudadanía por tanto voy acabando vuelvo a decir que nos felicitamos del acuerdo que hemos alcanzado para esta transacción

se haga de la forma en la que hemos aprobado en el día de hoy aquí eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos

la proposición y como se ha dicho aquí en las cláusulas suelo se establecía un umbral mínimo

situar el tipo de interés variable y a partir del año dos mil nueve como consecuencia de las sucesivas bajadas del euribor la activación de ese suelo motivó

y la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea de diciembre del año pasado ha puesto sobre la mesa una realidad compleja que afecta a un buen número de ciudadanos el gobierno de españa y las cortes generales han llevado a cabo iniciativas precisamente para hacer frente a los problemas surgidos

y los avances en esta materia como se ha dicho aquí también han venido de la mano de la regulación aprobada en europa en relación con la protección de los consumidores y los pronunciamientos

europeos es cierto como ha dicho el proponente que el tribunal supremo en el año dos mil trece declaró la nulidad de las cláusulas suelo en la firma de las hipotecas pero limitó la retroactividad

y distintos tribunales nacionales cuestionaron esta jurisprudencia del tribunal supremo ante el tribunal superior de justicia de la unión europea presentando distintas cuestiones

y así tres años y medio después el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis se dicta sentencia en la que se señala que la cláusula es nula es decir que nunca ha existido y que por lo tanto debe restaurarse la situación de hecho y de derecho ante

trajese consigo el incremento de demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las cantidades indebidamente pagadas el gobierno central consideró necesario y urgente arbitrar un procedimiento sencillo y rápido que permitiese una solución ágil y satisfactoria para el consumidor asumió la necesidad de crear un marco para atender una decisión judicial que podía afectar a más de millón y medio de españoles aunque es cierto que se trata de una regulación entre particulares no es menos cierto que debía de intervenirse por parte del gobierno en primer lugar

que iban a verse afectados y en segundo lugar porque iba a poder tener un importante impacto en un servicio público como era el de la justicia y se hace como se ha dicho aquí de manera rápida ya que la sentencia es de diciembre de dos mil dieciséis y se da respuesta en enero a través del real decreto ley

en el que con una regulación mínima se establece un cauce de carácter voluntario para el consumidor que le permita obtener una rápida respuesta a sus reclamaciones

cantidades indebidamente cobradas por esta el principal objetivo como decía de ese real decreto era establecer ese mecanismo de reclamación alternativo

judiciales y es voluntario repito voluntario para el consumidor afectado pero obligatorio para las entidades de crédito que deben ponerlo en marcha en el plazo de un mes las medidas previstas en este decreto facilitan el restablecimiento de los derechos de los consumidores en el plazo más breve posible

tener que acudir a un proceso judicial que se dilate en el tiempo pero eso sí dejando a salvo el derecho a la tutela judicial efectiva y si no quieren

es decir que este decreto lo que hace es crear primero una vía preventiva esa vía extrajudicial y

en cambio como decía es obligatorio para los bancos que en un mes como máximo deben informar y así se establece en el propio decreto deben informar

de reclamación y eso viene recogido en el real decreto la obligación de informar y el proceso además no puede durar más de tres meses se prevé una reducción también sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de las novaciones de contrato que pudieran resultar de la adopción de medidas compensatorias distintas a la devolución de efectivo

eso solamente es si el cliente lo desea porque se le da la posibilidad al cliente de que sustituya la devolución en efectivo por otros productos pero si el cliente no quiere esos productos y quiere la devolución en efectivo debe hacerse la devolución en efectivo

más adecuada y esto es así porque lo que se ha determinado es que se impone la condena en costas a la entidad

sea económicamente más favorable de lo que se había ofrecido inicialmente por parte de la entidad o bien no tiene que soportar

de la respuesta judicial por lo tanto ni es cierto que se cierre la vía judicial aquí no se ha dicho pero en el congreso de los diputados así se establecía que se cerraba la vía judicial

es cierto lo que se hace es penalizar a las entidades financieras en caso de que sean contrarios a la buena fe el decreto

habilita un órgano de seguimiento habilita al gobierno para establecer un órganos de seguimiento control y evaluación de las reclamaciones

consumidores y abogados y también en este decreto se regula el tratamiento fiscal concretamente en el irpf

de esta manera conseguir la neutralidad de esta medida y que los consumidores no se vean afectados vía impuestos tratamiento fiscal que efectivamente aquí nos corresponde a las

establecido con relación a la modificación de la ley hipotecaria señalar que por parte del gobierno ya se está trabajando en un nuevo proyecto de ley

se acordó con distintos grupos un decreto que se acordó hasta con cuatro grupos en el congreso de los diputados también con la ley hipotecaria se está hablando

aumente la transparencia de cualquier cláusula en un contrato de hipoteca porque de lo que se trata es de mejorar el funcionamiento del sistema hipotecario para

tal y como se ha hecho siempre en españa con relación a las distintas medidas que aquí se han puesto en la enmienda es

a última hora algunas de las cuestiones

son propias de aquí quiero decir que yo no veo en el congreso de los diputados instando a las diputaciones o instando

algunas de las cuestiones que se establecen en esa enmienda se pueden reclamar aquí en el parlamento vasco no en el congreso de los diputados otras cuestiones

es que como les digo ya se están haciendo aquí algunos el proponente y seguro que después vendrán también

pero desde luego lo que hay que reconocer es que el gobierno de españa reaccionó de manera ya digo la sentencia fue en diciembre y en enero el real decreto ley ya estaba y dando un procedimiento mediante el cual de forma también

los consumidores puedan recuperar lo indebidamente cobrado además

yo sé que cuesta mucho y por eso no está puesto en la enmienda pero también debiéramos felicitarnos por ese real decreto ley como digo acordado con muchos grupos y que resuelve
la cuestión a muchos consumidores nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

los trámites necesarios para la devolución de las cantidades pagadas de más por esta limitación que se impuso por la entidades bancarias en determinados prestamos hipotecarios ya se ha dicho no es un debate nuevo ni se puede afirmar que las instituciones se hayan mostrado neutras tal y como se menciona en la justificación

yo no voy a entrar aun a pesar de que igual se esperaba por algún interviniente que entráramos a discutir aquí los contenidos o defectos del real decreto ley uno barra dos mil diecisiete yo creo que ese es un debate que se ha producido ya en el congreso de los diputados que es el foro adecuado para ello también ha habido aquí ya algunas cuestiones que se han puesto de manifiesto por parte

así que yo creo que me voy a centrar más en el ámbito del gobierno vasco porque se decía que se instaba a dos ámbitos al congreso de los diputados por un lado al gobierno de la nación y por otro lado

no de ley se establezca en instancias o instar a distintos ámbitos no en cuanto al ámbito del gobierno vasco como les decía desde el departamento de turismo comercio y consumo a través de kontsumobide como muy bien han dicho se viene realizando una labor de asesoramiento de arbitraje y sanción

fecha desde la que se han atendido seiscientos veintiuno consultas y doscientos cincuenta y seis reclamaciones en esta materia en todas las reclamaciones que se han efectuado se ha procedido por parte

se ha logrado cerrar esta reclamación con acuerdo entre las partes el instituto vasco de consumo recoge en su página web como bien ha mencionado también algún portavoz un apartado especial

de la póliza del prestamo hipotecario firmado pasando por los criterios que están establecidos para declarar la nulidad de la cláusula por falta de transparencia

procedimiento que por cierto el establecido no fue modificado por la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea que se ha dictado en diciembre de dos mil dieciséis sentencia esta que ha desencadenado que hoy volvamos en este parlamento de las cláusulas suelo

ha sido corregir el planteamiento que en el año dos mil trece el tribunal supremo español estableció que era

las cantidades que habían pagado de más por la aplicación de estas cláusulas que consideró nulas pero les estableció un límite temporal que era la fecha en la que el tribunal dictaba su sentencia

esto no garantiza una protección ilimitada a los consumidores sino limitado y por tarto

en este parlamento de la retroactividad de las reclamaciones que se realizaban y desde cuándo porque en distintas instituciones se habló también de eso de forma inmediata a que se dictara esta sentencia el departamento de turismo comercio y consumo se hizo eco de la sentencia y en diciembre de dos mil dieciséis y a través de los medios de comunicación públicos recordó a usuarios y consumidores

para acompañarles en las acciones que quieran emprender para reclamar la devolución del dinero de las cláusulas suelo

en el caso de reclamaciones previas lógicamente a la vía judicial

de que el banco o caja ha podido cometer alguna infracción abrir un expediente sancionador para determinar su responsabilidad y en su caso si fuera necesario imponerle una sanción algo que tampoco es novedoso aunque lo incorporamos también a petición de eh bildu a la enmienda transaccional porque he de recordarles que fue hace ya unos años en el dos mil doce con una consejera socialista al frente de kontsumobide cuando se sancionó por primera vez a una caja

sanción que fue ratificada posteriormente por los tribunales contenciosos administrativos cuando esta entidad sancionada acudió en busca de amparo este parlamento tampoco

que siempre han concitado el acuerdo de los diferentes grupos como va a pasar hoy por mencionarles una el plan integral de inspección a las entidades de crédito que operan en esta comunidad autónoma y que a propuesta socialista se aprobó

que el gobierno tuviera una actitud activa aquí también ustedes lo han reclamado en una protección a las usuarias y los consumidores para que desde kontsumobide se comprobara si estas entidades financieras estaban procediendo de oficio a eliminar o a dejar de aplicar las denominadas cláusulas suelo y en caso de mantenerlas si aplicaban la transferencia suficiente para que la parte consumidora estuviera informada

como les he dicho antes y como les voy a recordar ahora en lo que nuestro grupo concierne y me imagino que a la mayoría de los que me han precedido y a los que vendrán detrás mío

en este tema como en otras ocasiones ya lo han dicho hemos conseguido llegar

entorno a este asunto hemos consensuado cinco puntos valoramos positivamente la sentencia creo que en eso hemos coincidido todos los que hasta ahora hemos intervenido solicitamos el impulso de medios de medios de control y mejora

nos decía la portavoz del partido popular que ya se está bueno lo que dice el real decreto ley es que se le habilita al gobierno para realizar este

si además está en su voluntad hacerlo no habrá dificultad tampoco en apoyarlo yo creo que se está en esta medida pero es que en ese órgano

en manos de los consumidores está funcionando correctamente

de medios de control y mejora como les decía que kontsumobide sigue implementando servicios de información y asesoramiento a las personas afectadas se hace sí se puede mejorar sí siempre se puede mejorar y por tanto apoyamos también que se incorpore en la transaccional

establecemos que se asesore a las personas afectadas por estas cláusulas

establece el tratamiento en régimen común de cómo tienen que tratarse las cantidades que se perciban por usuarios y por consumidoras en este tema

normativa fiscal vasca y por tanto deberíamos decir que neutros neutros pues no se ha sido yo creo que en cualquier caso

en esta materia seguir al lado de los usuarios y de los consumidores y por tanto y visto las intervenciones que hasta ahora me han precedido creo que sería posible

en el texto de lo que viene como dispositivo la actuación de nadie sino que décimos que se sigan impulsando medidas

al lado de los usuarios y de las consumidoras frente a los intentos abusivos de las entidades bancarias muchas gracias

a finales de los noventa había dos axiomas que marcaban la cultura

nunca pierden dinero y que el valor de la vivienda sube sine die

en los peores escenarios donde acaso se estancaba o bajaba de una forma muy suave muy gradual estos eran los principios básicos por los cuales se regía la inversión privada de la clase media vasca que lo que hacía era comprar la vivienda que tenían en propiedad la residencia habitual y en los mejores casos en los casos en los cuales tenían

participaciones en forma de acciones en blue chips en acciones de bajo riesgo que se consideraban de bajo riesgo del

o bien se invertía en una segunda residencia generalmente por

como quedó de manifiesto en la crisis económica que vivimos después aquellas dos frases que habíamos escuchando de gente que teóricamente era prudente yo una de ellas la escuché de boca de mi abuela por ejemplo

los dos axiomas fueron barridas de la realidad y de la

la banca no solo perdió dinero sino que se arruinó en muchos casos

sino que fue una bajada muy abrupta a partir del dos mil diecisiete que es cuando se inicia

en estados unidos y poco después en europa por tanto fue la misma crisis la que borró

estos dos axiomas estas dos afirmaciones quién iba a decir por ejemplo a un pequeño accionista del banco popular que por aquel entonces

que en el año noventa y uno su participación veintisiete años después es decir hoy valen lo mismo o un poquito menos

buruari hau dena gertatzen zen bitartean non zeuden cnmv comisión nacional de mercado de valores eta banco de españa delakoak

mala supervisión llevada a cabo por las instituciones públicas españolas quisiera aterrizar sobre el punto concreto de hoy que son las cláusulas suelo

por el tribunal supremo español estableciendo una no retroactividad y de forma más contundente y más clara después por los tribunales europeos que eliminan este principio de

abusivas y ante la perspectiva de una avalancha de denuncias que se esperaba

se aprobó en las cortes de madrid un real decreto el uno barra dos mil diecisiete al que han hecho referencia

las reclamaciones por dichas clausulas estableciendo una vía voluntaria y no excluyente

un trámite de reclamación una vía que pretendía ser más ágil rápida y gratuita que la litigante por vía penal dicho decreto empuja anima

de la cláusula suelo utilizando para ello como medida coercitiva

las costas judiciales que es una cantidad nada desdeñable sobre todo si tenemos en cuenta que hay millón y medio en el estado español en euskadipues evidentemente pues son alguna menos es cierto que nos hubiera gustado y así lo tratamos de negociar en madrid mi compañera idoia sagastizabal

incluyera la obligatoriedad de la banca de avisar de forma proactiva por parte de la banca hacia el consumidor y no y que el flujo de información no fuera al revés sus derechos y el cálculo

de dichas cantidades pero bueno no fue incluido en el texto

y por último solicitamos al igual que lo han hecho los anteriores

se ejerzan medidas de control sobre el funcionamiento del real decreto que a día de hoy y

eskerrik asko la verdad que no pensaba intervenir más allá de saludar

a nivel ideológico se han dicho aquí al margen del acuerdo porque señora

con el real decreto ley porque facilitar el papel de los bancos por ejemplo en el cálculo o que la información sea voluntaria porque no habla de individualizada habla de hacer unas campañas ese real decreto unas campañas de información es tanto como decir que es poner al zorro a cuidar a las gallinas porque es evidente que tiene una posición de fuerza una entidad bancaria frente a una persona que tiene una hipoteca que ha sido afectada por la cláusula suelo que bastante tiene con pagar la hipoteca de su primera vivienda como para encima haber estado pagando durante mucho tiempo más dinero del que

porque también el tema de los productos es decir en vez de facilitar y agilizar como dice el decreto

en productos financieros ese tipo de situaciones lo que hace es que se le ofrezca a los ciudadanos pues cosas posiblemente sí desconfiamos de los bancos salvo honrosas excepciones probablemente productos

rentabilidad para los clientes como por ejemplo preferentes o fondos de inversión a largo plazo a personas de edad avanzada etcétera etcétera por eso pensamos

más fácil mucho más ágil que se ingresase en metálico que se ingresase

creo que todo lo que afecta a euskadi se puede traer a esta cámara y también el real decreto ley afecta a ciudadanos y ciudadanas vascas y creo que también podemos

en ese sentido lo bastante no sé si la palabra es generoso o

ver lo que nos unía a la hora de aplicar ese real decreto ley

pienso que es necesario que ese tipo de cosas que afectan a euskadi como por ejemplo el debate del otro día del ceta o los debates que ha habido y habrá

también se puedan discutir aquí y señor arruabarrena

la verdad es que no estoy nada de acuerdo con la primera parte de su intervención porque lo que ha fracasado es el axioma

popular del capitalismo financiero del capitalismo especulativo de ese capitalismo que veía reducida su tasa de ganancia y lo que hacía es especular con el dinero de todos y de todas esa fiesta del crédito barato y de la especulación y los que se habrán arruinado en este país han sido miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas porque los bancos que yo sepa han quebrado algunos a otros los hemos rescatado con sesenta y uno mil millónes de euros otro ha sido rescatado en este caso concreto el de bankia

banca pública pero los bancos que han quebrado todos y cada uno de ellos han sido absorbidos por otros bancos los trabajadores en su gran medida despedidos y despedidas

financieras prácticamente casi todos de ellos y también aquí en euskadi si nos ponemos a hablar de capitalismo financiero y especulativo fracasado por mucho que los balances den bien también deberíamos de hablar de kutxabank líder de desahucios

en euskadi tendríamos que hablar de eso los balances serán todo lo positivos que queramos y no voy

se hacen en base a productos también por ejemplo como las cláusulas suelo a hipotecas con cláusulas abusivas

en desahucios y con críticas muy grandes por parte de las plataformas antidesahucios de que son

de los que menos facilita los procesos de mediación por tanto y acabo

con el acuerdo al que hemos llegado entre los cuatro grupos y también

por lo menos en la mayoría de los contenidos el partido popular pero bueno quería salir a rebatir

estamos lejos de llegar a un acuerdo en ese sentido eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

desde el escaño es verdad que aquí aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid se ha aprovechado por parte de por ejemplo del partido nacionalista vasco la mitad del tiempo más que hablar de la iniciativa

tampoco es nuevo y es algo que se hace habitualmente pero yo sí quería hacer alguna puntualización con relación al decreto hombre yo comprendo que poner en valor

no se acostumbra pero es que un buen decreto y cuando que favorece a los bancos pues yo por ejemplo quiero leer el artículo tres en el que dice las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa las entidades de crédito

tienen que efectuar el cálculo le tienen que comunicar al consumidor desglosando dicho cálculo y que en ese desglose además aparezcan las cantidades que corresponden en concepto de intereses y en la disposición adicional segunda cuando habla de la posibilidad de que se acuerde una medida distinta al efectivo en este caso la entidad de crédito debe suministrarle una valoración que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince días

y además requerirá que el consumidor haya recibido información suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver y la medida sustitutoria luego hay

y es mucho más beneficioso para el consumidor porque le evita tener que acudir a los tribunales y le permite cobrar de manera mucho más rápida y ágil luego yo ya comprendo que poner en valor algo que haga el gobierno de españa aquí no se acostumbra y menos desde grupos como podemos pero desde luego

no esperaba que incluyesen esa felicitación al gobierno de españa por la rapidez y el contenido de ese real decreto ley pero yo sí quiero que conste en acta desde este grupo esa felicitación nada más muchas gracias

estaba perfectamente explicado en el congreso y que pensaba centrarme en el ámbito más de la comunidad autónoma porque otros compañeros ya se habían centrado en ese ámbito yo lo único congratularme de que esto en vez de salir por mayoría salga por unanimidad porque yo creo que lo importante fundamentalmente es eso es decir llegar

de renunciar cada uno a las partes que traíamos en origen llegar a una transaccional ser capaces de sumar a todos los grupos de la cámara y dar un mensaje claro de que estamos al lado de usuarios y consumidoras frente a los abusos que quieran hacer las entidades bancarias

para decirle tres datos en primer lugar si tan malo es el decreto hombre el decreto fue publicado el veinte de enero

mes y ocho días para analizarlo y no aparece ni en la justificación ni en la proposición de ley por tanto en fin dedicarle tres barra cuatro partes del discurso y la mitad del tiempo de réplica y no dedicarle una sola palabra no una línea en la proposición no de ley a mí me llama la atención

en euskadi como ha dicho usted la bbk la kutxa y la vital no tienen cláusula suelo no las tienen por tanto

kapitalaren alde si hace siete años si en dos mil diez el reparto de las rentas entre el capital y el trabajo era un cuarenta y nueve por ciento

hoy nos encontramos con que se ha producido un gravísimo desequilibrio a favor del capital y la situación es cuarenta y seis cincuenta y tres es decir de toda la riqueza

recae en las rentas del capital y una parte menos se reparte entre los trabajadores vía salarios

si se quiere de carácter un poco teórico pero que creo que tiene su importancia y es que debemos constatar que existe una crisis de los sistemas tradicionales de medición de la salud

si antaño fijarnos en la evolución del producto interior bruto o en la tasa de desempleo nos permitía tener una fotografía aproximada con todas las críticas que se pueden hacer

tiene sus carencias pero básicamente medíamos así la salud de una economía y en función

o hablábamos de bonanza económica a día de hoy

de estos datos macroeconómicos el producto interior bruto y su evolución cada vez nos dicen menos de la situación real de la economía en una sociedad por lo menos de la economía de una mayoría y eso es así porque en los últimos años están siendo sistemáticamente menoscabados los mecanismos

de la riqueza porque se están abordando políticas restrictivas y esto es una ola global pero que también aquí tiene su eco en el ámbito de la fiscalidad a través de mecanismos de evasión de elusión y de imposición de políticas fiscales regresivas pero bueno eso como

hemos hablado y seguiremos hablando mucho de fiscalidad pero en el aspecto que nos ocupa

están siendo atacados de una forma expresa y luego veremos que además eso se sitúa en un contexto político de premeditación por tanto no sirve de nada decir que hay recuperación porque crece el producto interior bruto si esa recuperación no se traslada a una mayoría si esa es una recuperación simplemente de las cuentas bancarias

se nos dice bueno es que está creciendo el número de personas que tienen trabajo y eso efectivamente es así

la garantía que supone tener empleo sobre la garantía de que las personas

a las necesidades básicas en el aspecto material de sus vidas y por tanto estamos asistiendo también a la emergencia de ese fenómeno

pobres eso de que la mejor política social es el empleo se queda un poco cojo cuando entendemos que hay trabajadores y trabajadoras que tienen empleo pero que tienen que recurrir también a las prestaciones sociales como pasa con las más de doce mil personas que en esa situación

en esta comunidad por tanto podemos tener un crecimiento empobrecedor para la mayoría en el que crecen los datos macroeconómicos pero que el ciudadano de a pie el asalariado de a pie

en esta época de supuesta bonanza y recuperación los trabajadores y trabajadoras de este país cada vez tienen menos poder adquisitivo su salarios es cada vez valen para menos la mayoría cada vez es más pobre

porque hay quien quiere aplicarlo para maximizar sus beneficios y para imponer un mercado laboral

esos flujos que como si se tratara de meter una aspiradora en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras llevan el dinero de sus bolsillos a los bolsillos de los empresarios y de la patronal

y el responsable del bloqueo de la negociación colectiva y de la situación de deterioro de las condiciones laborales y de los salarios en nuestra comunidad somos críticos también con el papel del gobierno porque el gobierno ha secundado y ha hecho la ola de forma permanente a confebask ha sido mal patrón cuando le ha tocado cumplir ese papel y no hay más que ver que si hablamos de una tasa de precariedad del veinticuatro por ciento en la administración es del treinta y cinco por ciento o

en el sistema educativo y el gobierno también ha faltado al respeto al mundo sindical con críticas desaforadas y fuera de lugar y además respaldando acuerdos en minoría que no respetan las reglas de juego democráticas en el ámbito sindical gu gara oso kritikoak baina gaur ere etorri gara akordio batekin

horregatik ante esta situación de obvio deterioro del mercado laboral

entendíamos desde euskal herria bildu que era necesario tomar la iniciativa desde este parlamento hicimos en ese sentido un ciclo de comparecencias de los principales agentes en la comisión de trabajo y justicia y también realizamos una interpelación

de ese ámbito finalmente decidimos traer una moción en la cual proponíamos básicamente cuatro cuestiones un expreso rechazo a la reforma laboral la petición de una subida general de salarios la reivindicación de un marco vasco de relaciones laborales y una crítica directa a confebask por ser responsable de buena parte de esta situación evidentemente

pero como hemos llegado a un acuerdo lógicamente hemos tenido que incorporar voluntades y además hemos llegado a un acuerdo sin ningún tipo de complejo hemos llegado a un buen acuerdo porque existía la posibilidad

un acuerdo que nos obligaba evidentemente a limar algunos aspectos fundamentalmente en términos dialécticos de nuestra proposición pero que recogía básicamente de la misma y en ese sentido entendíamos que estamos en un momento en el que la situación es tan grave que más que buenos debates se nos exige a esta cámara acuerdos podíamos haber optado por el lucimiento por la confrontación por llevar

pero hemos entendido que existiendo la posibilidad de un acuerdo bueno es siempre mucho mejor que esa confrontación el acuerdo recoge lo esencial como decía la propuesta

al conjunto de la sociedad a los agentes sociales y sobre todo al agente social llamado confebask

no ha sido receptivo a este tipo de llamamientos porque se pide de forma expresa la derogación de la reforma laboral y se reconoce que esa reforma ha provocado precariedad y deterioro en las condiciones laborales porque se pide yo creo que esto es el titular del día de hoy se pide

porque se entiende que ese es el mecanismo para una adecuada redistribución de la riqueza y para una compensación de la pérdida de poder adquisitivo de las personas asalariadas en los últimos años y porque se pide que se levante el bloqueo a la negociación colectiva y a través de esa negociación colectiva se pueda emprender la creación de empleo de calidad y bien pagado

que tenemos en esta comunidad en el ámbito de las relaciones laborales entendíamos que era el momento de que ese mensaje se clarificara estamos convencidos de que este es el mejor acuerdo al que se puede llegar en esta cámara teniendo en cuanta y partiendo de la correlación de fuerzas existentes y por tanto tenemos que felicitarnos de haber sido capaces de poder materializarlo

claro es un mensaje que aunque no mencione responsabilidades porque evidentemente tenía que aunar el apoyo de diferentes sensibilidades políticas

de forma explícita y cosas muy importantes las deja claras también de forma implícita y se ve muy claramente quien es el apelado y quién es el interpelado por este

porque es la patronal la que está bloqueando la negociación colectiva y bloqueando los salarios y por tanto

anteriormente que nos gustaría verbalizar y verbalizamos a través del discurso

a determinadas actitudes del gobierno vasco y tenemos también otras cuestiones que seguiremos

criticando ese papel de confebask y su nivel de representación y su acreditación de esa representación exigiendo el respeto a las mayorías sindicales

euros exigiendo que la administración se comporte adecuadamente cuando le toque el papel de ser patrón y exigiendo y demandando

a la estatalización de los convenios y las relaciones laborales que no solo desde un punto de vista político sino desde un punto de vista práctico también va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras

egun on ante la iniciativa que se traía para debatir y hablar sobre el marco de relaciones laborales y sobre legislación laboral nuestro grupo entiende

otros grupos de la cámara que las relaciones laborales han sufrido profundas transformaciones y regresivas todas ellas en los últimos años

la de dos mil doce del partido popular pero también y así lo creemos la del año dos mil diez que hizo el partido socialista transformaciones

reducir los salarios para que las empresas compitan a base de reducir el gasto en mano de obra reducciones salariales o incrementos menores

se ha conseguido y se está consiguiendo mediante la sustitución de trabajadores indefinidos y con condiciones laborales más o menos aceptables por trabajadores temporales con contratos basura y en condiciones más precarias

son auténticos lobbies con contactos con la patronal y determinados políticos y fueron precisamente esos lobbies los que dictaron las últimas reformas laborales

y esto no lo dice solo nuestra coalición lo dijo

del ere de la todopoderosa coca cola quienes idean estas políticas

saben que para conseguir esos objetivos necesitaban acabar con las fuerzas de resistencia que suponen los sindicatos y de manera especial con su capacidad de maniobra en la negociación colectiva por la cual se establecen las condiciones de trabajo de las y los trabajadores por eso uno de loso objetivos concretos y fundamentales de las reformas laborales era atacar y acabar con las herramientas de las que disponen los trabajadores para organizarse y hacer frente a la patronal herramientas que son necesarias para equilibrar la correlación de fuerzas entre patronal y trabajadores

de forma previa y paralela a esas dos reformas laborales conocimos auténticas campañas de desprestigio de los sindicatos y sindicalistas

y lo que es peor se comenzó una autentica persecución contra sindicalistas por ejercer derechos fundamentales como el derecho de huelga la sucesión de reformas laborales emprendidas por los últimos gobiernos del estado generaron tres huelgas a nivel estatal y alguna más en euskadi a los gobiernos tanto del partido popular como del partido socialista y han dado por lo tanto como resultado esas reformas un modelo de relaciones laborales absolutamente desequilibrado y favorable a la parte patronal

un modelo que ha instaurado un estado de miedo en los centros de trabajo un miedo lógico ante la facilidad de un despido que no solo se abarata y subvenciona

un miedo al despido fácil además en un entorno de altas tasas de desempleo se hace realidad cada día en nuestras empresas la frase tristemente

de trabajo el viejo chantaje sobre la base del ejército de reserva del que hablaba carlos

más básica de las y los trabajadores en los puestos de trabajo tenemos un modelo de relaciones laborales que no concibe el equilibrio entre las partes y favorece en cualquier negociación

un sistema que debilita la participación organizada de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y busca la interlocución individualizada

haces esto o ya sabes lo que hay estas reformas laborales han dado como resultado que más del noventa por ciento del empleo que se genera tanto en españa como en euskadi sea precario temporal sin derechos así como que miles de trabajadoras y trabajadores sean empujados a la condición de falsos autónomos

además a estos se los etiqueta en las encuestas o en las estadísticas como emprendedores

además de explotación aquí hay cinismo las reformas han facilitado a los empresarios mantener y aumentar los beneficios a costa de los derechos laborales económicos y sociales

los niveles de desigualdad y pobreza dos reformas que han desequilibrado las relaciones laborales en favor de los patrones y han degradado las condiciones de trabajo y de vida

o empleos precarios como ya se ha dicho antes trabajar para seguir siendo pobres en muchos casos cinco años después de la última reforma laboral efectivamente la más dura las consecuencias no pueden ser más nefastas para las mujeres y hombres trabajadores la patronal

inmejorable en cuanto a las relaciones laborales una legislación y un marco de relaciones que les permiten tomar todas las decisiones y tener siempre la última palabra

es una espada de damocles sobre los trabajadores cuando se está negociando un convenio si no se llega a un acuerdo los trabajadores pierden sus derechos previos los de su actual convenio la patronal lo sabe sabe por lo tanto que puede chantajear a los trabajadores que o aceptan lo que la patronal proponga en última instancia o estos los trabajadores se ven abocados a peores condiciones la legislación

y han hecho que los trabajadores cada vez pinten menos en el establecimiento de sus condiciones de trabajo a la patronal más corrupta de europa se la premia con una de las legislaciones más favorables para imponerse en las relaciones laborales

por la crisis que el propio capitalismo ha provocado una patronal que tiene en estos momentos en la cárcel a varios de sus más ilustres representantes incluido el que fuera

de la que forma parte de manera absolutamente voluntaria la patronal vasca patronal vasca que está muy cómoda con esta situación la presidenta de la sala de lo social del tribunal superior de justicia del país vasco

se ha manifestado en varias ocasiones sobre las duras críticas que por parte de confebask reciben aquellos magistrados que aplicando la lógica jurídica

laborales por eso desde este parlamento nosotros pensamos que no podíamos ser timoratos o ambiguos y debíamos denunciar este estado de cosas y salir en defensa de las y los trabajadores que son la parte más débil en el ámbito de las relaciones laborales para nuestro grupo se trataba de aprovechar la iniciativa

de posicionarnos claramente con quienes han sido los páganos las auténticas víctimas de las políticas diseñadas y ejecutadas por los gobiernos no hay democracia en un sistema en el que quienes no tenemos otra forma de subsistencia que trabajar para otros no tenemos capacidad apenas para negociar esas condiciones de trabajo no se trata solo por lo tanto en nuestra opinión de revertir y de criticar que nos parece muy bien la última reforma laboral la más terrible la del partido popular pero la cual no hubiera sido posible sin la anterior porque las cosas en esta materia nos las van metiendo poquito a poco

nos parezca que no sufrimos y no se trataba solo de subir o de emplazar a subir los salarios nos parece esto nos parece bien pero no es suficiente porque incluso la patronal va a decir que no le parecen mal

pero siempre bajas y por debajo de las subidas de los precios y no nos parecía suficiente emplazar a que se desarrolle el acuerdo interprofesional es cierto que el acuerdo interprofesional sobre la estructura de la negociación colectiva es un punto de partida primordial pero no es suficiente dejar en manos de la patronal

la mayor parte de poder para determinar las condiciones de empleo

está claro para nosotros que está condenado al fracaso ojalá nos equivoquemos por eso es importante

en las mesas sectoriales respetando la ultraactividad indefinida de los convenios se trata de expresar claramente que el marco y la legislación laboral

nuestra propuesta pretendía que el parlamento y el gobierno vasco se posicionasen claramente en defensa de la parte débil en la negociación colectiva que son

parte mucho más débil por el resultado de la aplicación de las dos reformas laborales así como por aquellas adaptaciones que se han hecho en años posteriores en estos momentos

ser exigentes nos parecía que no era suficiente con el acuerdo que han alcanzado

nos parece que no debemos mantener una equidistancia entre agentes sociales para que en este terreno de juego se pongan de acuerdo porque creemos que el terreno de juego está viciado está dictado al servicio de una de las partes por eso

nos parece insuficiente el acuerdo al que se han llegado aunque es verdad que no nos vamos a oponer al mismo porque es un acuerdo de mínimos

una coalición como la nuestra no puede tampoco oponerse pero pensábamos de verdad que tal y como están las cosas y con las reglas de juego que se nos han marcado es hora de que los políticos también seamos más duros en esta cuestión porque la situación de las y los trabajadores es

ahora hay que debatir bajo la fórmula de moción sobre la negociación colectiva y las relaciones laborales un debate que yo ya intuía

interpelación cualquier esfuerzo por parte de la consejera de compartir planteamientos de explicar acciones compromisos o convicciones no nos iban a evitar que la moción llegara hasta el día de hoy

es decir que atañen a la negociación colectiva y a las relaciones laborales por eso hoy venimos a debatir de eso del marco de relaciones

se ha notado con conocimiento de causa seguramente de los que intervinieron de forma previa

parlamentaria a los sindicatos de esta comunidad y a varias patronales

como en el ámbito europeo que han provocado que los trabajadores y las trabajadores hayan perdido parte de sus condiciones laborales

y al núcleo básico de la negociación colectiva yo sé a ciencia cierta que el señor casanova más allá del discurso encendido que en esta tribuna suele utilizar

es un asunto que implica e incumbe a los agentes sociales

de la parte empresarial y que ambas partes tienen autonomía en el ejercicio de esta materia y que por tanto son los responsables de desarrollar la negociación colectiva y que la misma dé los frutos oportunos

a impulsarla para que las partes logren acuerdos o por lo menos en lo que se refiere al gobierno vasco distinta cuestión es si nos elevamos al gobierno central creo que es necesario que esta premisa que es sencilla quede meridianamente clara desde el principio porque es desde esta premisa desde esta base desde donde hemos podido llegar a un entendimiento

nacionalista aunque estoy segura de que compartimos también en un porcentaje muy amplio el análisis de la situación de la negociación colectiva en euskadi que nos relataba la consejera de trabajo en el pasado pleno de control y que en algunas cuestiones hoy se ha repetido en esta tribuna

los convenios han decaído se ha cambiado radicalmente el sentido hemos pasado de ámbitos más amplios y garantistas de negociación colectiva a la negociación precaria empresa por empresa un diagnóstico que compartían los sindicatos hemos podido escuchar en sus comparecencias cómo nos decían

a modificar la estructura del modelo de negociación colectiva de distribución de renta y de poder en las relaciones sociolaborales

y las cláusulas de inaplicación han roto el equilibrio negociador necesario y han dado un mayor poder al empresario a la parte siempre ya más fuerte de la relación laboral y esto en perjuicio de quién va pues no hay duda

por qué porque estos pierden el paraguas de los convenios de los marcos de negociación más amplios donde tradicionalmente se han conseguido las mejores condiciones las condiciones más ventajosas que por cierto

negociaciones en los convenios empresa por empresa se partía siempre del convenio sectorial

el ámbito de protección algo que parece sencillo de entender o a mí por lo menos me lo parece pero no debe serlo tanto porque no lo entienden así tampoco todas las fuerzas sindicales

han abrazado esta teoría de que es mejor cubrir a los trabajadores uno por uno con chubasqueros en vez de colocar una gran lona que les proteja a todos han abandonado a nuestro entender la responsabilidad que en labor de la defensa de los intereses de los trabajadores están llamados a ejercer

no se están implicando en impulsar procesos de negociación de mayor cobertura como son los convenios sectoriales o territoriales no discuto la virtualidad que puede tener un convenio de empresa pero desde luego no puede estar a la altura nunca de un convenio sectorial o territorial

que no se debe perder de vista que la reforma laboral ha dado la vuelta como un calcetín a nuestro mercado laboral que ha desregularizado el mercado ha impuesto la ley del más fuerte

y sin lugar a dudas para qué para dificultar o incluso impedir la consecución de nuevos acuerdos y que para hacer frente a esta situación yo creo que hay que partir de dos premisas y hay que saberlas decir también en tribuna no solo en privado también en privado es decir por un lado necesitamos que se recupere la unidad de acción sindical para que la patronal

único y fuerte y por otro lado la patronal debe tener la certeza de que se va a producir un cambio legislativo que revierta esta situación y que restablezca el equilibrio

lo primero le compete a los sindicatos lo segundo nos compete a nosotros a nuestros compañeros en el congreso de los diputados hay una mayoría suficiente para hacerlo y buena prueba de ello es el apoyo que se ha dado en el congreso de los diputados hace escasos meses

la del doce atacó directamente la negociación colectiva y eso no hay duda

que no funcionaron o que no cumplieron los objetivos con los que se pensaba que se realizaban y que por tanto habrá que revertirlo y en eso supuestamente

la negociación de un nuevo estatuto de los trabajadores pero ahí lo que tenemos es la posibilidad de derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo estatuto

pero si nos centramos en euskadi aquí también tenemos unas herramientas que son eficaces para desarrollar un marco de

un modelo de negociación colectiva con características específicas herramientas que son eficaces pero para que sean útiles tienen que ser utilizadas tienen que ser usadas y ese es el empeño que desde del departamento de trabajo de la consejera de trabajo se nos intentó trasladar en el pleno de control

e insistir y favorecer en que se abran vías de concertación para lograr el objetivo de que en euskadi

puedan acogerse o estar protegidos por un convenio que se haya firmado en esta comunidad autónoma y para ello para nosotros ya he oído que también para otros de los que me han precedido es un punto de partida primordial el acuerdo de estructura firmado el pasado diecisiete de enero por todos los sindicatos y la patronal

sí pero llega ahora y vamos a aplicar el refrán popular más vale tarde que nunca yo creo que es un acuerdo que puede ser útil pero para que sea útil

del cierre de acuerdos entre los protagonistas de los mismo que no son más que sindicatos y patronales

el parlamento lo que hoy hace desde unos principios mínimos que hemos conseguido consensuar es que haga un llamamiento a las dos partes de la negociación

unos insistirán más en la patronal otros hablarán también de los sindicatos pero al final el parlamento insta a las dos partes

reactiven la firma de convenios de ámbito vasco que permitan unas condiciones más justas

consiga que esa recuperación económica que parece que está llegando a las grandes cifras también llegue al bolsillo de la clase trabajadora porque ese concepto de

no podemos permitir que se quede o que se instale en ese sentido no ha sido timorato ni ambiguo el acuerdo al que nosotros hemos

de este parlamento a este primer paso de enero y con esto concluyo le vamos a sumar el acuerdo político de hoy que yo creo que es importante ellos han hecho un esfuerzo por firmar ese acuerdo en enero

queremos darle la importancia porque nos gustaría que todos los agente sociales entiendan que tienen el apoyo político institucional para buscar ese entendimiento para proteger los derechos laborales que son una demanda que realizan además los trabajadores y las trabajadoras y que además nosotros creemos

y como los socialistas lo entendemos así quisiéramos que lo que hoy respaldamos también termine por abrir las puertas a la mesa del diálogo social con la foto completa los intervinientes que se reúnan cuanto antes porque nosotros lo necesitamos y los trabajadores de la calle todavía

señor casanova de que usted es especialmente estricto con los parámetros del debate

las justificaciones pero en este caso y atendiendo un poco sobrevolando los planteamientos del debate que planteaba o vinculado a la interpelación

a la parte dispositiva de su moción entendíamos que nos planteaba un esquema

que trasciende efectivamente esa justificación de la interpelación por ello presentamos una enmienda de totalidad también siguiendo ese esquema que usted nos planteaba escenario actores y esquemas de fondo análisis estrategias propuestas nos parece indispensable también en esta cuestión hacer una mención cronológica ya que entendemos que este debate va mucho más allá de esa mera interpelación insatisfecha a la que usted hacía referencia

y su consiguiente moción para nosotros es esencial también recordar que usted también lo ha hecho hoy

implicados en esta cuestión que fechaba usted en febrero del diecisiete y el desarrollo de las propias comparecencias que se produjeron entre el diez de marzo y el veinticinco de abril el esquema de nuestra

el escenario el escenario como ya se ha comentado aquí ese escenario normativo ese escenario normativo que se ve recogido en su moción se ve recogido

y nosotros en nuestra enmienda y que se ve recogido también en el texto transado nuestra posición respecto a esta cuestión o a este primer punto

y reiterada en el tiempo nuestra coherencia en esta cuestión es indudable materializada en nuestra posición de voto en el congreso tanto en mayo del dos mil diez como el junio de dos mil doce la

nos parece esencial es algo tremendamente positivo a nuestro juicio los actores los agentes

entre titulares de las relaciones laborales y otros agentes

es decir los representantes de las trabajadoras y de los trabajadores y los representantes de las empresas tienen especiales responsabilidades de las que no pueden evadirse

algo sobre lo que usted hace hincapié el gobierno vasco el gobierno vasco tiene que tener implicación por supuesto que tiene implicación y

la vemos en el ámbito de nuestra formación en su programa una implicación que tiene reflejo también en el acuerdo entre partidos y una implicación que tiene también sin duda un clarísimo reflejo en el programa de gobierno

con compromisos concretos en esta cuestión reforzar el sistema vasco de relaciones laborales compromiso concreto promover el diálogo social a través de la creación y el impulso de un órgano permanente

que manifiesten como no podía ser de otra manera su voluntad de participar institucionalmente en el mismo

laboral y la competitividad empresarial fomentar compromiso de fomentar la participación institucional de los agentes sociales y desarrollar su papel como protagonistas del diálogo social y el compromiso de impulsar la participación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas

reforzando los programas de apoyo económico e incentivos fiscales orientados a este objetivo

sensibilización y difusión en la sociedad vasca de los beneficios de esta participación son compromisos claros son compromisos claros de este gobierno

el análisis el análisis y atendiendo también a ese aspecto cronológico a mi juicio el núcleo de nuestro texto

de enmienda y del texto también acordado es el acuerdo del diecisiete de enero

esencial de este acuerdo y a mi juicio también es el núcleo que aparece en las solicitudes

registra el veinte de febrero del dos mil diecisiete usted nos habla en esas solicitudes de una realidad negativa en el ámbito vasco de relaciones laborales

pero dice usted y le cito pero no todo es negativo en su justificación pero no todo es negativo el pacto

un hito yo también comparto esta cuestión

a los que van a acudir a esas comparecencias que nos presenten análisis propuestas realmente a mí me pareció algo ilusionante señor casanova ilusionante este planteamiento suyo qué es este acuerdo qué es este acuerdo porque estamos hablando del acuerdo y a veces nos olvidamos de lo que es el acuerdo de diecisiete de enero primero está firmado

por las organizaciones empresariales y por los cuatro sindicatos más representativos de euskadi y con un objetivo claro hacer prevalecer los acuerdos

a los convenios estatales defensa de nuestro ámbito defensa de nuestro ámbito

fueron pasando los días y fuimos viendo las comparecencias

en el último marzo pasado han ocurrido cosas pero quiero trascender un poco de estas cuestiones que fueron ocurriendo utilizando ese comentario que usted hacía entre discurso y acuerdo y potenciando el planteamiento de acuerdo pero no le voy a ocultar que

muy muy decepcionado por ustedes y soy y quiero ser también crítico un poco con ustedes a mi juicio ese es el núcleo ese es el núcleo el acuerdo es el núcleo de esta cuestión que usted nos trajo y el acuerdo diecisiete de enero desaparece en alguna de esas comparecencias en una en concreto y el acuerdo del diecisiete de enero desaparece en el texto de su moción

un acuerdo que usted nos trae que desaparece y que vuelve a aparecer y que vuelve a aparecer en el texto

que hemos firmado realmente para mí es una estupenda noticia

nuestra posición en el acuerdo firmado pues realmente en el párrafo primero lo he comentado nuestra postura respecto a ese escenario normativo sin duda alguna el párrafo segundo al que usted decía o sobre el que usted decía que iba a ser el titular de la prensa bueno realmente yo repasando las intervenciones de diferentes agentes a lo largo de las comparecencias

los procesos en los que han participado hemos negociado y ha habido alzas en el ámbito salarial

reamente para mí el titular es la aparición del acuerdo de

como partida primordial como se dice en el texto como partida primordial para

y señor casanova la pelota no está en el tejado de solo de uno la pelota está en el tejado de todos

gracias señora presidenta miembros del gobierno señorías buenos días a todos efectivamente en las últimas semanas hemos visto pasar por la comisión de justicia y de trabajo a diferentes agentes sociales representantes de la patronal representantes de los trabajadores y si en algo podemos coincidir en el debate que tenemos hoy esta mañana es que el diagnóstico que todos ellos han hecho es que el diálogo social está muerto

inexistente y en un estado de salud muy precario ellos son los que dan diferentes adjetivos para poder definirlo bien y calificarlo por lo tanto no voy a perder ahí el tiempo la situación es muy mala tampoco hacía falta que vinieran ellos a contárnoslo porque es algo que cualquiera que ponga un pie en la calle

va a conocer inmediatamente y eso lo compartimos todos lo que yo no puedo compartir

a ese problema aquí se dice que la solución a ese problema es inmediatamente derogar la reforma laboral se decía inicialmente

laboral al completo claro la del diez y la del doce

muy grande muy profunda y que además inmediatamente se infecta y

los efectos de la reforma fue la destrucción de tres millónes y medio de puestos de trabajo posteriormente hubo que hacer otra reforma que no digo yo

pero los efectos de la reforma del diez y la del doce no son los mismos de la destrucción de tres millónes y medio de puestos de trabajo a la creación de empleo de reducir un dos por ciento al año a la afiliación de la seguridad social a que crezca un tres coma cuatro

pues el cambio es evidente de que crezca el índice de desempleados de este país en un diez por ciento todos los años con el gobierno socialista a que a partir de ver los efectos de la reforma laboral se cree empleo a un nivel del doce y ahora

anual respecto de esos índices de desempleo pues el cambio es completamente distinto no se puede meter en el mismo saco la herida la motosierra y el bisturí porque desde luego son diferentes y por tanto yo me tengo que oponer a esa derogación total de la reforma del estatuto de los trabajadores y es que estoy seguro el lehendakari nos

ese análisis y posiblemente sus consejeros tampoco la reforma no hay que derogarla se podría mejorar se podría modificar bien

la iniciativa que nos han presentado en la enmienda de totalidad de los grupos que sustentan al gobierno dicen que se modifica un poquito el estatuto de los trabajadores hombre

una enmienda conjunta pero a veces es igual mejor no decir nada que decir cosas que no tienen ningún sentido porque me encantaría que ustedes el grupo socialista y el grupo nacionalista instan a que se reforme el estatuto de los trabajadores en el congreso de los diputados

firme artículo tal punto tal artículo tal apartado cual esto lo reformo y esto lo he modificado firmado de la mano partido socialista y partido nacionalista vasco les doy no seis meses seis años a que no lo presentan seguro que no

son diferentes unos están más con la motosierra y otros están más con el bisturí que ha hecho daño evidentemente que se ha destruido empleo evidentemente pero hemos dado la vuelta y las cosas están funcionando empleo precario empleo horroroso bien en el dos mil siete más o menos el sesenta y cinco por ciento de los

en el dos mil diecisiete el setenta y cinco por ciento tres de cada cuatro trabajadores tiene empleo indefinido luego hemos mejorado eso es empleo precario bueno eso son puntos de vista sinceramente que yo no puedo compartir con ustedes y las condiciones salariales cuando

resulta que nos estamos acercando o hemos superado perdón el salario medio de la unión europea pues parece ser que los empleos y cada vez son más

y cada vez cobran más pues no serán tan precarios esos nuevos empleos que se están creando que insisto habrá que mejorar

pero con proposiciones serias y con proposiciones positivas porque si

nos hubiéramos centrado en el tema de la ultraactividad o por qué se ha dado mayor

a usted señor casanova le ha quedado muy claro después de todas las comparecencias que hemos tenido

exigir a confebask que se siente a negociar a mí me ha quedado claro

que tanto asociaciones empresariales como sindicatos dudan de la legitimidad de confebask porque dicen que no es la más representativa puede ser no lo sé no tengo una opinión profundamente formada al respecto pero luego le echamos toda la culpa a confebask que por cierto no vino pero a mí me quedó muy claro

ahí que es que si vamos a sentar por un lado a la patronal y por otro a los sindicatos

no es que no exista unión es que no tienen ningún interés en que exista ni la va a haber

que es que no me siento ni a hablar es curioso

el ámbito de la negociación privada de los convenios colectivos al público y quitamos a confebask que no está y ponemos al mayor empleador de este país que es el gobierno vasco

y si nos olvidamos la petición del incremento de los salarios porque eso va por ley

los sindicatos lo tienen claro hay acuerdos pues no tampoco igual es que la culpa no solamente es de la patronal igual es que también es la culpa del gobierno

hay decenas de miles de trabajadores de este país que vive del erario público de las aportaciones que hacemos todos a través de nuestros impuestos y desempeñan un trabajo fantástico por supuesto que sí

tenemos que culpar exclusivamente a los empresarios o a los grandes empresarios que parece ser por lo que decían que es a los que representa confebask esas peticiones

no sé son como sueños y mañana que se sienten que aprueben una subida de los salarios

euros pues claro que lo queremos todos por supuesto que sí y ojalá fuera más por supuesto que sí ahora se ha planteado usted a la hora de hacer esa petición

la secunda si nuestro tejido productivo lo soporta todos sabemos que no todos sabemos que eso es imposible

cuánto tiene que ser el salario cualificado

empresarial productivo puede soportar eso el nuestro no luego hacemos

y yo he dicho cosas absolutamente imposibles de hoy para mañana por lo tanto yo sí les pediría por favor un poquito más de concreción

igual es mejor que haya más parados igual a algunos les interesa que haya más paro y que haya más pobreza porque en ese totum revolutum pueden triunfar igual a nosotros nos preocupa la marcha del país la marcha de las familias la marcha de las empresas y la marcha de los trabajadores y creo que la derogación de la reforma

la solución de ese problema y por lo tanto no podemos apoyar de inicio esas propuestas que han hecho entre los tres grupos ni culpar a unos

de sentarse en las mesas de negociación ni de llegar a acuerdos ni entre a ellos ni a quienes tienen que ser los que ocupen el otro lado de la negociación

y el privado y como me estoy quedando sin tiempo pues en la segunda parte trataré de explicar la posición en el acuerdo

a la patronal que no se habla del gobierno y que ya no se deroga la reforma laboral sino que

al sol es importante llegar a acuerdos pero a veces cuando el acuerdo cambia por completo la iniciativa de origen y de los cuatro puntos que uno presenta

le voy a desgranar el acuerdo y verá que no es así que no se ha quedado en cero sino que la sustancia sigue estando ahí y sigue estando ahí con bastante claridad la mejora

pero no ha sido gracias a sus políticas ha sido gracias a un cambio de ciclo global usted decía la crisis

la recuperación es gracias al pp sí la de portugal también y la de alemania y la de toda europa y la de todos los países

ustedes no son artífices de la recuperación macroeconómica su responsabilidad sus políticas y su reforma laboral lo que han conseguido es que esa recuperación macroeconómica

a la ciudadanía y que esa recuperación haya sido para unos y para otros

y lo mismo podemos aplicar a la cuestión de las relaciones laborales claro un observador externo dice

y habrá que repartir las responsabilidades pero aquí cabe aplicar también el principio aquel de cui bono quién se está beneficiando

laborales y están viendo bajar sus salarios y los empresarios cada vez ganan más hombre

los que están imponiendo el bloqueo porque además ustedes han puesto en su mano

para que puedan hacerlo y señora castelo y señor aiartza parece que

al hilo de la interpelación hombre creo que tendrían que felicitarse porque gracias a esta moción

a la sociedad y sobre todo a quien corresponde y tiene que hacer oído ante lo que estamos hoy aquí discutiendo y aprobando

como si fuera un punto débil de mi argumentación si ese acuerdo efectivamente lo recogíamos en la presentación de la petición de comparecencias como uno de los hitos positivos y desde el primer momento

que se estaba instaurando en la sociedad y al que contribuimos precisamente en clave positiva

pero coincidirá conmigo en que hubo unanimidad en todos los comparecientes en este parlamento en señalar que ese acuerdo era bueno pero que ese acuerdo era solo un punto de partida que ahora había que llenar de contenido y efectivamente es lo que apelamos en este acuerdo a que se llene

voy a formular las cosas de una manera que nos podamos entender porque si yo le digo al gobierno que se ponga del lado de la mayoría trabajadora usted me dice no no el gobierno tiene que ser neutral yo le digo bueno

a favor de los trabajadores como ha sido neutral a favor de confebask hasta ahora

algunos sindicatos están fuera de la realidad por este país y por la recuperación solo trabajamos el gobierno y la patronal

no hace mucho yo pido que esa misma neutralidad a favor de confebask ahora la haga a favor de la parte que es mayoritaria y que además tiene razón y trabaja por el bien común y no por el beneficio de una pequeña minoría como lo está haciendo confebask y se me acaba el tiempo para desgranar el acuerdo pero yo creo que el acuerdo primer punto rechaza la reforma laboral e insta

se reconoce que hay una devaluación y precarización y se pide la derogación de las normas que han llevado a ello que se restaure el equilibrio se reconoce que no hay equilibrio que contribuya a recuperar derechos

que es lo que no se está creando solo eso en el punto uno fíjese si se dicen

a ustedes a los dos el parlamento considera

y no hay unanimidad no hay consenso cuando décimos que hay que subir los salarios de forma generalizada

no somos partidarios de subir los salarios de forma generalizada literalmente

no vamos a aceptar el planteamiento de quítame la reforma laboral y aquí décimos

hombre yo creo que aquí hay quien se siente interpelado y que se siente ratificado por otro lado en los planteamientos sindicales de denuncia de estas actitudes y cuando al final décimos que el acuerdo interprofesional se tiene que desarrollar que hay que dar prioridad al ámbito vasco

yo creo que esto no es un brindis al sol he reconocido evidentemente que como en cualquier acuerdo

pero considero que está sustancialmente reflejado lo fundamental la derogación de la reforma laboral la subida de los salarios y la reanudación de la negociación colectiva que actualmente está bloqueada por decisión unilateral de confebask en ese sentido a partir de ahora los sindicatos

tienen el apoyo moral de este parlamento y tiene el apoyo moral de esta cámara para reafirmarse y para tener un instrumento más de presión para conseguir sus justos objetivos me congratulo que hayamos podido llegar a este acuerdo

el hecho de que confebask no quisiera participar

en la comisión de trabajo y justicia

cómo está esta cuestión que veníamos aquí a debatir de la negociación colectiva y del marco de relaciones laborales no necesitaba venir a esta cámara

porque no necesitan decir nada están absolutamente cómodos porque como yo he intentado explicar en mi anterior intervención

para desarrollar la negociación colectiva por la que se establecen las condiciones de trabajo de las y los trabajadores es en estos momentos unas reglas de juego

a explicar nada ni a pelear nada porque saben que en estos momento tal y como están las cosas respecto al marco legal les

saben que las condiciones de trabajo que se negocian siempre son en última instancia las que la patronal vaya a aceptar

ahí sí que no se van a dejar pelos en la gatera porque como he explicado antes las reformas laborales y yo no venía aquí desde luego a hacer tampoco sangre igual lo ha parecido sobre la reforma laboral del partido socialista creemos que esa reforma laboral fue nociva fue negativa por una serie de cuestiones que explicamos y no tenemos ningún problema al contrario agradecemos escuchar a miembros o parlamentarias del partido socialista decir que aquello tuvo cosas

eso lo agradecemos incluso agradeceríamos más si como en algunas otras cuestiones se reconociese que aquella reforma laboral no debía haberse llevado a cabo independientemente de que luego se pueda explicar que se hizo en determinado contexto etcétera nosotros

y trabajaríamos para ir al fondo de la cuestión que es

como el resto de cuestiones que componen el marco legal que tenemos ahora mismo están construidos para la patronal y hay que construir uno nuevo nosotros cuando leímos la iniciativa

hablaban de un marco propio exclusivamente y tal y otros grupos pues quizás no estemos tan de acuerdo con eso y pensamos que hay otras fórmulas marcos compartidos etcétera porque pensamos que el fondo de la cuestión o lo que nos preocupa es el contenido de ese marco

geográfico del mismo nosotros estamos de acuerdo en la importancia de los convenios sectoriales desde luego nosotros pensamos que como he dicho antes no pudiendo oponernos a una serie de cuestiones mínimas que ustedes

pensamos que esta cámara debería haberse posicionado de una forma más valiente y pensamos que el partido socialista puede ir más allí pensamos que si no puede ir es porque está en un acuerdo de gobierno con el partido nacionalistas vasco pensamos que podía ir

que en la anterior legislatura o en el año dos mil trece creo que era la anterior legislatura todavía se aprobaron también en esta cámara pues algunas cosas que aunque fueran de manera temporal iban más allá

de lo que hoy se aprueban nosotros pensábamos que el reconocimiento o la instancia a la ultraactividad

pues pensamos que hubiera podido ser una manera en la que el partido socialista hubiera ido más allí y nosotros hubiéramos estado más cómodos a la hora de firmar un acuerdo que como digo no nos oponemos a él no es que nos opongamos a él es que tal y como están las cosas en las relaciones laborales nos parece absolutamente

en cuál quiero que sea el titular vengo pensando en defender mis posiciones con mayor o con menor acierto y sabiendo que también

pero que vengo a defender unas posiciones y nosotros pensábamos creemos

se posiciona reiteradamente de una parte que es la parte patronal

y en cambio para la parte sindical solamente tiene réplicas para decirles de vez en cuando que no hagan política etcétera

nos parece que esta cámara tendría que posicionarse claramente yo sí lo digo de la parte débil

de que necesitamos un nuevo marco de relaciones laborales porque el que hay no sirve y ahí nosotros desde luego trabajaremos en el congreso de los diputados por eso reitero mi grupo se va a abstener ante esta propuesta eskerrik asko

bueno voy a empezaros leyendo qué nos decían en los sindicatos coincidían pero cojo

al salario y también fruto de la pérdida de los convenios hemos tenido a veces que priorizar la defensa del ámbito del propio contenido y especialmente de los contenidos en materia salarial me dice ha habido una pérdida de poder adquisitivo en aquellos convenios que no se han llegado a firmar llevamos muchísimos años

en base a que esto es un dato que se nos repitió en las comparecencias viene motivado el porqué el punto dos de nuestra enmienda de ese acuerdo de mínimos que por cierto podríamos ir más allá yo no sé si tengo que ser más valiente pero el que no ha sido valiente para estar en la foto con nosotros igual ha sido el portavoz de elkarrekin podemos porque si hemos quedado tan justos o tan cerca o habría que ir más allá

y luego haber dicho en esta tribuna que usted hubiera ido más allá pero es que a veces hay que ir a lo común

a las centrales sindicales y a las patronales a los dos

nos olvidamos del otro si implicados están los dos y protagonistas son los dos sí que es cierto uno tiene mayor poder que otro

de la negociación colectiva en la situación que tenemos jurídica y de establecimiento desregulado de las relaciones laborales es con la unidad sindical enfrente del empresario y eso hay que hacérselo entender a ellos porque es lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras para tener

porque si no está muy bien que hablemos aquí pero el que no tiene protección el que no tiene que exigir o el que no tiene que poder ir a reclamar es aquel que no tiene un convenio colectivo que le resulte de aplicación entonces bueno la patronal está cómoda sí pero también otros grupos se han mostrado cómodos y no hemos sido capaces de

mensaje yo creo que la confrontación dialéctica es buena la hay se ve perfectamente cuando intervenimos aquí que desde el partido nacionalista eh bildu partido socialista

de llegar a eso lo ha explicado el portavoz de eh bildu lo que pedimos es que se deroguen las normas contenidas en la reforma laboral que hayan devaluado y precarizado las condiciones de empleo y lo hemos especificado así precisamente porque en el congreso de los diputados sobre el cual le voy a recomendar

porque ya se ha tratado allí una proposición sobre el estatuto de los trabajadores y ya se ha dicho por dónde se tiene

no estableciendo la relación de artículos y con un proceso de participación con quién con quien tiene que luego tener su aplicación y quiénes son los que sufren con ello que son los agentes sociales no es una cuestión de que

sino que eso se haga desde la participación con los agentes sociales y viendo aquello que funcionó y aquello que no porque fíjese usted cómo es que de aquella propuesta original elkarrekin podemos pidió que se salvara una parte de la reforma del año dos mil doce relativa a medidas de conciliación

pues mire usted usted ha dicho motosierra sabe lo que metieron ustedes en el dos mil doce a la negociación colectiva dinamita pura y dura en la base

se la cepillaron el partido popular se cepilló la negociación colectiva le dio todo el poder a la patronal eso es lo que hizo por qué

esa estadística oficial ya me gustaría verla a mí si la tiene que no tenga el sello del partido popular nos la hace llegar porque es no le voy a decir que lee usted mal los papeles porque como no los ha bajado no ha podido yo creo que lo importante aquí y más allá de criticar a veces yo no sé si les duele que se lleguen a acuerdos o tal hemos intentado

no queremos necesitamos una reforma del marco regulatorio porque esto también hará que la patronal se mueva en su voluntad de negociar necesitamos que en el marco de la negociación colectiva se establezca en este momento la importancia de una subida de salarios que palien

de las personas asalariadas y creemos que es importante que desde aquí se reconozca la importancia del acuerdo firmado por los sindicatos y la patronal en enero creemos

ese apoyo también desde aquí a ese acuerdo y les pedimos les instamos a los dos patronal y sindicatos a todos los sindicatos a todas las patronales que llenen de contenido

que de ahí ya den el salto y lleguen a la mesa de diálogo social todos para poder ahí marcar cómo tiene que
terminar o como tiene que desarrollarse nuestro marco de relaciones laborales eskerrik asko

decía el señor casanova parece que no nos gusta este debate yo le aseguro que me gusta

otra cuestión es que le haya indicado que lo trae un poco

de una interpelación cuya respuesta a su juicio es

por eso lo que he querido es contextualizar y decir no no el debate es mucho más profundo tanto en lo referido a los contenidos como en lo referido a la cronología pero

sobre todo porque el debate nos permite eso nos permite avanzar conociendo las posturas de cada uno es la esencia del debate

otra cuestión que ha comentado es la petición de neutralidad petición de neutralidad se dirige al gobierno pidiendo neutralidad lo que han hecho

o la imagen que nos traslada que sea neutral el gobierno yo creo que es una

y yo le he hablado de cuáles son los compromisos del gobierno la obligación y la implicación del gobierno es crear las condiciones parece que usted con esa imagen dice que en función de cómo el gobierno se mueve o vaya hacia un lugar o hacia otro puede

el gobierno el gobierno lo que está implicado en crear las condiciones así lo dice y así lo está haciendo crear las condiciones

en las que se pueda dar una auténtica negociación colectiva crear las condiciones y luego ya entrando más en detalle en algunas cuestiones

del acuerdo y para no alargarme más señor ruiz de arbulo derogar dice usted derogar la reforma laboral

y derogar aquellas normas contenidas en la misma que han devaluado y precarizado las condiciones del empleo es sustancialmente diferente es sustancialmente diferente hay otra cuestión relacionada con el párrafo segundo con el punto segundo del acuerdo

es el escenario en la negociación colectiva todo pasa por el escenario en la negociación colectiva se puede hablar de esto se puede discutir sobre esto

en la negociación colectiva es la esencia del párrafo segundo en la negociación colectiva que tiene mucho que ver con lo que comentaba con el el núcleo a mi juicio de esta cuestión que es el acuerdo del diecisiete de enero que no voy a repetir más ese carácter nuclear

y ahí sí que instamos claramente a que y les instamos a todos a todos los agentes a los titulares a los que más por su responsabilidad a qué les instamos a que se desarrolle y se

esa es la esencia de este acuerdo un acuerdo que por otra parte para nosotros como no puede ser de otra manera

vemos reflejado sin duda nuestra posición creo que es

no son gracias a los gobiernos del partido popular y que está creciendo toda europa eso es matizable eso es muy matizable

mucho más rápido que el resto de europa e instrumentos

en otros países porque han visto que la receta era buena y que el resultado del enfermo es muy bueno que ha mejorado mucho

me dice usted que aquellas personas que a diciembre de dos mil trece habían perdido su empleo

han recuperado el empleo a mayo de este año esas personas no han notado que las cosas van mejor porque sus derechos sindicales igual no son lo que a usted le gustaría pues mire francamente yo creo que a una persona que está en casa que no puede alimentar a su familia

que no puede participar y desarrollar un proyecto de vida el tener o no tener trabajo es fundamental

generar empleo y es lo que se ha conseguido les guste o no les guste y ahora cambiamos una palabra del acuerdo de todos y ahora matizamos un poquito y ahora miramos para otro lado y décimos que

los resultados son buenos y ha merecido la pena vamos a modificarla y vamos a actualizarla fenomenal para eso están trabajando en el congreso de los diputados señor hernández le había entendido mal en el primer turno pensaba que decía que no quería usted llegar a un

y me ha sorprendido porque yo leía el acuerdo y decía pero si esto es precisamente absolutamente ambiguo y absolutamente timorato ya he visto cuando ha explicado su posición de voto que prefiere quedarse fuera

conforme con la iniciativa que usted ha planteado como me sorprende que esté el señor casanova que ha venido aquí a criticar la postura del gobierno a criticar la postura de la patronal ni el gobierno

generalizada de los salarios en qué condiciones eso es como no decir nada señor casanova

en su intervención de verdad ha subido hizo el otro día una interpelación dura a la señora consejera

un buen discurso duro fuerte y después firma un acuerdo que realmente no dice nada y por eso precisamente nos vamos a quedar fuero de ese acuerdo

decir que estamos en las antípodas de eh bildu y las suyas en políticas de empleo creo que es un alago inmerecido por la intervención que he tenido hoy muchas gracias

la situación en la que se encuentra el programa de gestión solidaria de libros de texto un programa que lleva en marcha desde dos mil siete que es abierto

una cuota de uso por unos libros que pertenecen al centro y que se debería renovar cada cuatro años pues bien con el argumento de la transición

el departamento ha decidido eliminar las ayudas al prestamo de libros

una decisión que desde elkarrekin podemos creemos que no es acertada

si esta decisión no es acompañada de otra decisión de inversión

ya sean tablets u ordenadores portátiles que permitan al alumnado

una decisión que puede derivar en que unas familias puedan permitirse pagar o comprar estas herramientas pero otras familias no

y es a esto a lo que nos referimos

puede contribuir a generar brechas entre el alumnado y por la que presentamos entre tanto esta iniciativa a veces no es solo cuestión de falta de recursos sino de una gestión no adecuada de los mismos

estamos a punto de finalizar el curso y se sigue sin conocer cuáles son los planes del departamento de educación para el curso que viene en lo que se refiere al programa de materiales didácticos impresos o digitales así como al proceso de digitalización de los centros educativos

entre la ciudadanía brechas referentes a la disponibilidad o no de herramientas tecnológicas relativas al conocimiento sobre su buen uso

consideramos que es de suma importancia asegurar y evitar que estas brechas digitales no se trasladen a las aulas dicho de otro modo

que la tecnología no se convierta en un elemento discriminatorio al fin y al cabo detrás de esta iniciativa está el derecho a una educación de calidad para todos y para todas eta esan behar dut bukatzeko pozten naizela

gracias señora presidenta venimos aquí

que se ha firmado entre el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular el grupo popular mejor dicho aquí todos somos grupos desde luego la reflexión que ha traído

más interesante y más necesaria nosotros habíamos hecho una enmienda que expresábamos aquello que creíamos que no trataba la enmienda de elkarrekin podemos y que era necesaria de todo punto

yo creo que todos coincidimos que las tecnologías

son el futuro de la educación y es que son el futuro de la vida diaria de hecho

que a mí me da un poco de preocupación porque es un futuro que está pasando ya nos está pasando y eso quiere decir que nuestro presente se convierte en pasado

entonces preparando este tema he estado viendo todo lo que se ha estado haciendo

y miren la verdad es que me he quedado bastante confundida estoy segura que para los que han estado trabajando en ello todo estará muy claro y todo estará muy bien pero piensen ustedes en un profano

no un profano ignorante sino un profano que verdaderamente quiere entender y se encuentra con modelo de madurez tecnológica

no sé si es una errata o es que la cercación es algo es algo no la cercación cercación de madurez tic se entiende muy premia berriztu

y todo ello según una contestación de la consejera basado en el plan vasco de informática educativa que es de hace

de hace tres décadas y nosotros lo que queremos es que a ver si conseguimos simplificar esto y hacer algo simplificado

los partidos del gobierno que dice el parlamento vasco insta al gobierno

las necesidades de la digitalización yo creo que aquí falta una palabra que es tras el análisis de las necesidades de digitalización

a la propuesta de un plan de digitalización integral de las escuelas vascas eso nos parece bien a ver si conseguimos que ese sea el plan

el simplificado el que nos ayude a todos y podemos no voy a decir olvidar porque seguro que serán muy importantes pero subsumir todo esto los modelos de madurez tecnológica la cercación

porque a lo mejor es una errata y es la creación pero no creo que es algo porque aparece en muchos sitios y no creo que sea una errata que se haya cometido muchas veces sare

ikastola dos punto cero y sobre todo que nos olvidemos de ese plan vasco de informática educativa de hace tres décadas

ya vamos para treinta y tres años por favor nosotros verdaderamente le pedimos a la consejería de educación que haga ese análisis y nos traiga un plan de digitalización único que por supuesto aproveche todas estas experiencias pero que dejemos de tener esto como una maraña

muchísimo también y por eso lo hemos introducido en esta enmienda que es la formación del profesorado

en la primera enmienda de elkarrekin podemos hablaba de proporcionar me imagino que tablets o algo así a todos los alumnos

para qué sirve eso siendo muy importante para qué sirve eso si los profesores no están absolutamente capacitados para utilizarlo como una herramienta que mejore lo que hacen ahora entonces la compra de tablets

que viene sería bueno que fuera simultánea pero incluso posterior porque lo principal es que nuestro profesorado pueda esa herramienta luego había otras cosas que metíamos en nuestra enmienda pero que las hemos retirado no porque no creamos que sea importante creemos que es fundamental necesitamos un universo único educativo para todo euskadi un universo que permita

que convivan en él todos los profesores convivan sus experiencias necesitamos mantenimiento de ese universo porque vamos todos sabemos que al final muchas veces los informáticos nos dicen apaga y vuelve a encender

tener un mantenimiento para todo ese universo pero todas estas cosas que habíamos metido hemos pensado que

introducirlas en ese plan de digitalización porque lo que no podemos hacer es una enmienda en el que pidamos un plan de digitalización y ya estemos diciendo

son fundamentales estén dentro del plan de digitalización y como hablamos de traerlo como una propuesta esperamos poderlo enriquecer entonces

que para nosotros tan importantes ahora bien la formación del profesorado creemos que no puede esperar por eso la hemos añadido y desde luego lógicamente nuestro grupo va a votar

queremos recordar que nos hemos marcado como reto la modernización la modernización de la infraestructura informática de los centros para posibilitar

ágiles y seguras que posibiliten conseguir un verdadero centro educativo en red continuaremos dentro del plan premia que crece en el capítulo segundo de veintiséis mil a doscientos seis mil con el plan de reposición de equipos a través

e iniciamos e iniciaremos la ampliación de dotación de pizarras digitales a los cursos de primaria que no disponen de ellas

todo ello conlleva un incremento

lo que supone un incremento del cincuenta y siete por ciento orduan

bien nuestra sociedad está claro que tiene y necesita mayor conocimiento y siempre va a necesitar más

está en este caso directamente relacionado con la generación de conocimiento

se basa en la interacción entre la persona y la máquina y la utilización de manera intensiva de las nuevas tecnologías digitales de información y comunicación

escepticismo pero no podemos negar que la realidad es la que es que las tecnologías avanzan y hay que adaptarse sí o sí al mundo digitalizado

siempre además ante los cambios la sociedad ha tenido dos actitudes los que se han resistido y los que se han convertido en pioneros de ese cambio y ahora estamos ante un cambio importante del que efectivamente hay que decir que no partimos de cero y no tenemos que dejar nada atrás se han puesto en marcha

pero es evidente que hay que dar un paso más en la modernización tecnológica de la educación vasca definitivamente y alcanzar el consenso de todos de toda la comunidad educativa

en un plan de digitalización tenemos la obligación de conectar la escuela de manera profunda con la transformación tecnológica de esta sociedad para que la escuela tenga autoridad

debe adelantarse al medio social en el que nuestros estudiantes viven y se desarrollan y hay muchas razones para avanzar la primera es la igualdad tenemos que combatir

y además tenemos que procurar que todos nuestros estudiantes vascos accedan a los bienes de este mundo igual porque no todos los niños y niñas pueden disponer en su entorno familiar de esas herramientas y la educación vasca lo que tiene es que garantizar la igualdad de oportunidades en las aulas para poder competir de igual manera y que esto no se vea influido por los motivos económicos que pueda tener

la segunda es la enseñanza personalizada es muy difícil para un profesor con veinticinco alumnos mantener el ritmo y la tensión dialéctica que precisa un aula cuando tiene veinticinco ritmos de aprendizaje diferentes

a la hora de hacer que ningún niño que sea más lento para el desarrollo de sus destrezas se quede atrás y que ningún niño más rápido en el desarrollo

es un fracaso y la tercera razón sería la extensión también del euskera en la red

lo que es aceptable y lo que no y además necesitamos que tengan competencia técnica

su competencia profesional en los medios informáticos

puede ser fundamental en sí mismo para avanzar en equidad social y salvar eso que hablábamos de la brecha digital un foso social y económico

y a la comunicación sino que también tiene que ver con la utilización correcta de esas tecnologías y más allá en el propio acceso al conocimiento también hay que tener presente que preservar nuestro patrimonio lingüístico propio y cultural pasa por expandirse al mundo digital la generalización de las tecnologías digitales

podrán suponer en el caso del euskera un incremento sin duda alguna de su uso comunicativo en la enseñanza vasca se han registrado algunos pasos importantes en la implantación de las nuevas tecnologías digitales de la información

diversos planes y programas realizados durante estos años pero es cierto que no es desde luego suficiente y que hay que progresar más y situar como objetivo

en todas las escuelas públicas esta perspectiva implica la dotación de equipos en cantidad y en calidad suficiente y las ampliaciones en la conectividad de los centros escolares que desde luego no es la ideal en estos momentos hay que convertir a las tecnologías digitales

y aprendizaje es verdad que se han dado pasos y es verdad decía la señora ubera la segunda pata del bipartito de la oposición

parte de los compromisos o de los ambiciosos planes que se plantearon en un momento pero es verdad que yo creo que la enmienda que se presenta

un compromiso que se dirige hacia el gobierno para que este plan de digitalización llegue cuanto antes a este parlamento tenemos experiencias anteriores con desarrollos diversos

proceda a la apuesta en marcha de un plan de digitalización integral algo con lo que

de lo que son las meras herramientas informáticas debería convertirse en un asunto clave del departamento de educación la modernización de nuestro sistema educativo en igualdad de condiciones para todos los alumnos y alumnas y para todas las escuelas públicas vascas así tendremos una educación de calidad

que sin duda le servirán para un futuro laboral cada vez más exigente

beste alde batetik iruditzen zaigu pues que nuestra propuesta es una propuesta de carácter general y lo que queríamos

un debate y sobre todo comprobar la voluntad política que hay en esta cámara y además diseñar un plan

porque es cierto como decía el señor pastor se han hecho cosas por supuesto lo que pasa que lo que tenemos que hacer es ordenar todos los planes

en un único plan que sea el que se implante en todos aquellos centros de la comunidad autónoma del país vasco y por tanto

que debe estar actualizado y sobre todo lo que decíamos que recoja un análisis previo el análisis previo es comprobar que la situación de los centros

en un pueblo en un centro grande en un lugar donde existe un porcentaje muy elevado de alumnado de otros orígenes

pues las situaciones son diferentes las realidades son diferentes y por lo tanto el plan que se vaya a poner tendrá que reforzarse

estén más débiles la cuestión es que dentro de nuestra iniciativa destacamos dos cuestiones una que el plan

en la educación pública pero no porque estemos contra la concertada ni muchísimo menos es porque la pública está en situación más débil

hay que subvencionar por supuesto hay que financiar la escuela pública vasca independientemente de que no deseamos mal a nadie y por supuesto no deseamos ningún mal

un plan que ponga especial énfasis como decía en la educación pública

este cambio de paradigmas y también queremos un plan que se haga por supuesto de manera consensuada con la comunidad educativa

evitar que la tecnología se convierta en un elemento que discrimina entre los centros

entre las posibilidades socioeconómicas de las familias eta horregatik berriro esaten dizuet ez dakit zergatik ez dugun

de las cosas que se han dicho aquí sí que me gustaría comentar algunas cosas la señora ubera siempre con ese retintín yo no sé si piensa

le voy a decir una cosa señora ubera si el grupo popular estuviera en un tripartito nosotros tendríamos una silla aquí

libres de analizar cada tema y poder pronunciarnos y esa es nuestra satisfacción y nuestro orgullo usted siga con sus pequeñas mezquindades que además hacen mucha gracia

pero para nosotros es un orgullo porque somos absolutamente libres de decidir nuestra postura vamos a ver hay una cosa que nos gustaría recordarle al gobierno

que esperemos que el grupo parlamentario se lo traslade y es que europa concedió dos millónes y medio

para que los distribuyera entre las comunidades autónomas para conseguir una conectividad de alta calidad es más el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis lo anunció el mismo gobierno vasco la firma de un convenio

todavía no ha firmado ese convenio es un dinero europeo que se reparte a través del ministerio de educación y la noticia es del propio gobierno vasco

una pena que mientras el resto de comunidades autónomas tiene ese dinero precisamente

para una actuación para mejorar las redes la conectividad en educación

no la utilizáramos y por último quiero decirle a la señora pili zabala

de que según usted su enmienda prácticamente decía lo mismo recogía lo mismo bueno aparte de no estar de acuerdo con eso

no sé si por ingenuidad o por qué hemos querido darle

y si la consejería de educación se compromete a hacer un plan de digitalización y a proponerlo porque si usted lee es a traerlo como propuesta

determinar si su contenido es el idóneo o faltan cosas nosotros también como usted sabe en nuestra primera enmienda habíamos puesto muchas más cosas que creíamos que debían figurar en este ámbito ahora bien precisamente para no volver a crear

ya digo el que sepa como el señor urrutia que nos ha demostrado que sabe exactamente

denominaciones pero precisamente para no seguir emborronando con programas programitas

nosotros queremos darle una oportunidad a ese plan de digitalización examinarlo

ver lo que debe ir en ese plan y lo que no debe ir

porque como he empezado a decirle y seremos severos y lo reclamaremos porque como le he dicho a la señora ubera nosotros tenemos un privilegio que es

para no estar atados por nada ni por nadie para decidir sobre los temas eskerrik asko

pero que persisten en la segregación eta

de titularidad pública para evitar que la tecnología se convierta

priorizando los centros de titularidad pública para evitar que la tecnología se convierta en un elemento segregador